egoeran laguntzeko trabajo solidario y comprometido en defensa de la salud

centenares de vascos y de vascas y de organizaciones de la solidaridad de euskal herria israelek ere bai

armadaren partetik israel el estado de israel acusa a juana ruiz

ilegal además un tribunal militar que no es un tribunal civil rechaza la libertad condicional de la cooperante de nuestra compatriota de la solidaridad israel

la cooperación la solidaridad el hermanamiento entre pueblos realiza una acusación directa de colaboración con el frente popular de liberación de palestina partido

hay que denunciar que tanto israel como estados unidos y la unión europea lo considera una organización ilegal cuando es una organización legítima de parte del pueblo

legebiltzarretik juana ruiz

el gobierno de españa y la unión europea deberían trabajar y deberían presionar

una situación en estos momentos en los territorios ocupados por la entidad sionista de israel

al grito de matemos a los árabes ataques a los lugares santos como la explanada de las mezquitas alentadas por los partidos que sustentan al gobierno

que vuelve a ser desalojado para ocuparse por colonos una ocupación que volvemos a denunciar como ilegal y por supuesto lo todavía más sangrante de todo que son los bombardeos del estado de israel

sobre los edificios de los medios de comunicación internacionales situación que ha causado más de doscientos personas muertas

niños y niñas incluidas y una situación de devastación absoluta

además que ya estaba sufriendo un brutal bloqueo en lo que podemos llamar la mayor cárcel del mundo

volver a denunciar al estado de israel sus políticas de apartheid su violación de todos los derechos humanos

bajo administración de israel como la que vive bajo administración de la autoridad nacional palestina que sufre las políticas

por parte del estado de israel por eso vuelvo a decir algo que me habrán oído decir más de una vez

es un primer paso hay que ser firmes con el estado de israel y hay que avanzar a una situación en la que no podamos normalizar unas relaciones que no pueden ser normales con un estado que practica como política de estado el apartheid de

nos suena mucho a otros momentos del pasado y por tanto no podemos seguir estando de forma silenciosa de forma oficial de las instituciones europeas permitiendo a israel que haga todo este tipo de atrocidades por tanto volvemos a reclamar momentu honetan juana ruiz kooperantearen

en las que viene trabajando juana ruiz efectivamente viene trabajando en los comités de trabajo para la salud sobre todo en prevención de salud en mujeres y niños en esa zona de cisjordania y gaza donde está promoviendo la prevención sanitaria vacunando a niños y niñas de jerusalén este que es

se ha negado sistemáticamente a vacunar lleva salud natal y prenatal a las mujeres de sobre todo también realiza campañas de información formación

y singularmente en aquellas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y lo digo porque efectivamente también existe un intergrupo en este parlamento en este sentido y

de pacientes en catorce clínicas que tienen

insisto en ellas porque son digamos difícilmente

delito alguno como lleva afincada tantos años como también señalaba

considerada residente se le está aplicando como a todos los palestinos

esto significa que no hay derecho civil que valga y que por lo tanto se traduce además en que se puede prolongar la prisión preventiva administrativa durante más

entrando en la situación policial o de detención de juana hay que decir que después de varias comparecencias telemáticas desde el día trece que se le detuvo el día seis de mayo compareció ante el tribunal militar israelí más de veinte días como digo de detención se le acusa de pertenecer a una organización ilegal ya lo ha comentado también el señor

fondos de la cooperación internacional para sostener esta acusación

los investigadores militares israelíes pergeñan una maraña

viene participando en una red que introduce ilegalmente

popular de liberación de palestina mediante fraude y engaño a los donantes

yo creo señorías que todos conocemos que en euskadi y en españa también sabemos mucho de cooperación internacional nuestras instituciones han mantenido siempre un compromiso importante con la solidaridad y en los últimos treinta años ha habido un desarrollo se ha experimentado un desarrollo extraordinario en lo que al incremento de recursos destinados a este fin se refiere

a la solidaridad y a la cooperación internacional no solamente a nivel de la administración central también de las comunidades autónomas de las corporaciones locales y también entre la sociedad civil del impulso de esos valores de cooperación y solidaridad internacional a través de programas y proyectos de sensibilización

y hay muchas actividades e iniciativas en relación con la cooperación y con la defensa de los derechos humanos

durante tantos años hemos aprendido muchas cosas y la canalización de la acción humanitaria oficial se realiza mediante procedimientos de concesión subvencional muy muy muy rigurosos lo cual nos puede permitir afirmar

de evitar cualquier desviación de manera que las afirmaciones que la investigación militar israelí sostiene en estos momentos no se sustentan

porque deben de carecer también de la base mínima indiciaria desde el punto de vista jurisdiccional aunque sea militar porque la realidad es que juana a fecha de hoy se encuentra detenida sin cargos y sin ninguna imputación concreta

el derecho internacional y supone una gravísima violación de sus derechos fundamentales pero es que además israel hace otras cosas que es

la normativa internacional concretamente incumplido entre otros el artículo treinta y seis de la convención de viena sobre las relaciones consulares que está

que obliga a informar sin retraso alguno a la oficina consular de españa en este caso de la situación de todos sus nacionales

puestos a disposición de prisión preventiva o detenidos y también habrán de informar sin dilación acerca de los derechos que les asisten me estoy refiriendo a los detenidos nada de esto se ha producido en el caso de juana y además no solamente eso sino es que hoy

en realidad la situación de juana ruiz bueno señorías en realidad una de las señas

hemos tenido una labor ingente e ininterrumpida en el compromiso en la puesta en valor de la cooperación y la solidaridad internacional y de la defensa de los derechos humanos y por tanto

de iniciativas de denuncia pública como la que hoy nos ocupa yo por mi parte tengo que trasladar la preocupación y la condena sin paliativos de los socialistas vascos por las constantes violaciones no solamente en israel sino en muchos otros lugares

que se producen violaciones de derechos humanos que se producen en múltiples como digo rincones del planeta

se encuentren donde se encuentren puedan disfrutar plenamente de sus derechos y desde luego

significa también defender a los defensores de derechos humanos que es la iniciativa original que estamos debatiendo

obviamente y con mayor fuerza cada día a crecientes niveles de persecución e intimidación y violencia como es el caso de juana

a debate esta proposición no de ley por la vía de urgencia lo que pasa es que la situación pues siempre supera la realidad y mientras la vida es eso que pasa mientras tú tienes otros planes pues ocurre lo que ocurre

un desarrollo de una situación señorías que todos conocemos que es cíclica en cualquier caso lo que pretende este parlamento es

la condena de esta detención arbitraria y justificada tanto de la

y exigir la aplicación de las normas del derecho internacional público del derecho internacional humanitario y la salvaguarda de los derechos humanos voy a ir terminando y creo que es

la postura y la posición de los socialistas vascos siempre

y quiero nombrar expresamente a mi compañero mikel unzalu

en derechos humanos muchos años y ha dejado clara cuál es la posición del grupo socialista y nos corresponde insistir y lo que queremos hacer

es fundamentalmente aparte de condenar la situación que están sufriendo todos los palestinos y especialmente juana

instar a la comunidad internacional a una implicación decidida para poner al conflicto retomando las vías del diálogo y la negociación denunciando y rechazando de manera contundente la ocupación ilegal

de los territorios ocupados mostrando insisto nuestra solidaridad y compromiso con los derechos humanos y llamando a intensificar los esfuerzos

una solución del conflicto justa y duradera solución señorías que pasaría por el reconocimiento del estado palestino las fronteras de mil novecientos sesenta y siete

el reconocimiento mutuo de los estados es la única solución para acabar

y sobre todo para poder ver un futuro de respeto de los derechos humanos en este caso de los derechos también de todos los cooperantes que trabajan allí y concretamente de juana yo creo que no es poco pero tampoco ni más

committees y contra juana ruiz y sus compañeros detenidos exigimos

y por supuesto toda la solidaridad de este grupo y este parlamento con ellas eta beraiei buruz ari ginela eta

irabazi asmorik gabeko erakunde honen helburu bakarra y lo décimos rotundamente condenamos firmemente esta detención arbitraria de la cooperante juana ruíz cooperante que lo único que hace es salvar vidas además de juana también detuvieron ese fatídico trece de abril a tayseer abu sharbak

responsable actual y anterior del departamento de contabilidad

teniendo siempre presente que las detenciones se produjeron sin cargo alguno incumpliendo el derecho internacional

no de ley es mostrar nuestra firme condena al arresto arbitrario de juana ruiz sánchez y de sus dos compañeros tayseer abu sharbak y saeed abbad de la organización sanitaria palestina health work committees

acusación sobre esta trabajadora humanitaria vulnerando las normas mínimas internacionales de respeto por los derechos civiles y políticos

que trabajan en ayuda humanitaria no solo en palestina sino en el resto del mundo queremos mostrar nuestro apoyo a los y las familiares de juana ruiz y sus compañeros

labor que realizan por salvar vidas en este caso

lehendakari consejero consejeras bien como

parlamentario popular ciudadanos lo que tenemos que hacer es agradecer sin duda el trabajo de tantos cooperantes de tantas ongs y tantas organizaciones como la efectivamente con la que estuvimos la semana pasada reunidos en aquella parte del mundo y haciéndolo ámbitos como la educación o la salud o la cooperación al desarrollo y en ese sentido pues hay una posición previa desde luego

que traen a colación que trae esta iniciativa parlamentaria demuestran que es una situación complicada y preocupante no nos gusta desde luego lo que pasa lo que está pasando y no nos gusta esta situación pero nos falta algo para pronunciarnos definitivamente o contundentemente como lo hace la iniciativa no y nos la tiene que dar nuestras autoridades nos la tiene que dar si hay algo que nos falta nos la tiene que dar esa información al final y al cabo o sea ver qué gestiones diplomáticas

nuestra embajada de españa en israel o el ministerio de asuntos exteriores aquí en españa o el alto representante para la política exterior de la unión europea el señor borrel

lógicamente ese tiene que ser el primer pronunciamiento que asumamos

pronunciarnos nos preocupa es muy preocupante dos cosas ya lo han dicho ustedes muy preocupante y a nosotros también como grupo parlamentario nos inquieta dos conceptos que salen en esta situación

y prisión sin cargos efectivamente es

no puede ser que esto se mantenga así y desde luego no nos gusta pero bueno hemos tenido que presentar una enmienda a la totalidad efectivamente por esa

análisis previo a la actuación que tengan que hacer nuestras autoridades

en la zona o en el ministerio de asuntos exteriores o en la unión europea por eso hemos hecho una enmienda que ante la situación de detención de la ciudadana española

permanencia prorrogada en prisión sin cargos por decisión de un tribunal

nosotros lo que hacemos es solicitar precisamente al ministerio de asuntos europeos de españa

primero de la situación de la ciudadana española y que adopten las medidas oportunas para esclarecer los motivos de la detención sin cargos

y a que exijan a las autoridades israelís una explicación clara de la situación cuestión que hasta la fecha no se ha producido por eso mismo nosotros

las autoridades diplomáticas en españa o

en medios de comunicación que los observadores jurídicos diplomáticos que han seguido de cerca el caso sostienen que no se han respetado garantías procesales que se ha incumplido la convención de viena sobre asistencia consular lo ponía de manifiesto la señora gallástegui bueno pues por eso mismo más que nunca es necesario un pronunciamiento del ministerio de asuntos exteriores de españa saberlo y para que nosotros también si esto es verdad y todo esto ha sido así

cuál es el paso y con qué contundencia diplomática e internacional pueden actuar en esas cuestiones lo que tenga que hacer

será lo que nosotros asumamos es una cuestión delicada

es lo fundamental es achacable en primer lugar a las autoridades de israel pero nosotros pensamos que para pronunciarnos sobre cuestiones que afectan a la actuación de un estado democrático como lo hace la iniciativa debemos tener más información por parte de las autoridades diplomáticas consulares y de exteriores de nuestro país o de la unión europea eso es un elemento fundamental de referencia que a nosotros nos servirá desde luego para pronunciarnos definitivamente y desde luego nosotros

es suscribir los esfuerzos de la unión europea

complicados y difíciles en este momento como lo estamos viendo o a través de los esfuerzos del alto representante de la unión europea de sus predecesores que también

en el marco de lo que el gobierno de españa haga en sus relaciones diplomáticas exteriores y en este caso con israel o en el marco de lo que la unión europea y sus instituciones

gracias señora presidenta señorías otra vez nos vemos debatiendo una iniciativa que excede de nuestras competencias

ustedes en vez de preocuparse de nuestros problemas de los que sufrimos los vascos quieren ahora solucionar los problemas de venezuela de cuba de honduras de colombia ahora nos traen el conflicto entre israel y palestina no se equivoquen estamos aquí para hablar

y para ustedes además que tanto reclaman la autoridad de sus competencias de las suyas esto debería ser muy fácil de entender pues bien señores del gobierno grupos que sustentan al gobierno

de verdad creen que los ciudadanos vamos a entender que en este parlamento

piden ustedes la liberación de la cooperante juana ruiz sánchez detenida por presuntamente desviar fondos europeos

terrorista por estados unidos canadá y la unión europea al fin y al cabo aunque su nombre sea rimbombante como lo fue el movimiento de liberación nacional vasco

además de detener a juana ruiz sánchez están también detenidos los dos encargados de la contabilidad y se han requisado los equipos informáticos para su revisión

para vox no es sorprendente que bildu se apoye en esta causa y se sume a ella pero que otros tres grupos del gobierno y otros tres grupos parlamentarios den por sentado el juicio sin siquiera haberse celebrado

dejen hablar a los jueces es curioso además que el señor tellería en el pleno anterior para defender a la consejera de salud utilizó el argumento de que no se había celebrado juicio dijo textualmente la oposición sentencia antes del juicio pero entonces en esta cámara sí se estaba tratando una cuestión que entra en nuestras competencias sin embargo ahora les parece lícito pronunciarse a favor de la liberación de juana ruiz sánchez antes de que concluya el proceso judicial en curso

como lo fue calificar a bildu pp y vox como el trío de colón por coincidir

por el contrario la foto del cuarteto del cordón esa de su partido con bildu podemos y psoe es ya parte de nuestro paisaje político todos se erigen en defensores de los derechos humanos en esta iniciativa y lo hacen junto a bildu en su punto uno vienen a reivindicar el respeto de los derechos políticos

en nicaragua en timor en el kurdistán en cualquier lugar del mundo menos aquí en su propia casa donde violan

de vox una formación política legal eso sí muy distantes de sus postulados señorías del cuarteto del cordón

antes de limpiar la de los vecinos cojamos la escoba para resolver nuestros problemas los reales los que tenemos los vascos los del empleo la salud la seguridad en nuestros barrios la ocupación el bienestar de nuestros mayores la inclusión en el mercado laboral de nuestros jóvenes la educación de nuestros niños tenemos muchos pongámonos manos a la obra señorías y como dijo napoleón

emateko no es la primera vez que debatimos sobre la atención primaria sin duda a lo largo de esta pandemia de este largo año

que todos los sistemas sanitarios pueden tener y el nuestro

a cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema sanitario a nadie se le escapa que ocupa un lugar clave en el sistema sanitario en la atención sanitaria

en el que se realizan mayoritariamente los diagnósticos el seguimiento también de los pacientes que han sido diagnosticados

el cuidado de los enfermos paliativos y también todo lo que es la red de salud mental por lo tanto son muchas cuestiones las que aborda la atención primaria y todos y vaya aquí también mi reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y en este caso como estamos debatiendo sobre la atención primaria a los que prestan su atención en este nivel asistencial como decía en euskadi tenemos vigente una estrategia de atención primaria nosotros cuando ya se debatió la pasada legislatura en y se presentó tuvimos ocasión de manifestar algunas deficiencias que entendíamos que tenía dicha estrategia y en ese sentido nosotros en nuestra enmienda

estrategia en esta estrategia en euskadi se plantean siete líneas estratégicas revalorizar el papel y la función de la atención primaria adecuar las estructuras de los equipos de atención primaria los retos demográficos y

optimizar la organización y gestión de los equipos de atención primaria profundizar en el desarrollo profesional relevo generacional y consolidar un modelo de atención pediátrica entre otros

más relevantes sin duda

todos somos conscientes del papel fundamental de la atención primaria y que es necesario reforzarla muchas de las cuestiones se han puesto aquí encima de la mesa y no me voy a repetir una de las cuestiones fundamentales y que siempre también

teniendo es la falta de recursos humanos suficientes para prestar una atención de calidad y sobre todo

se agudiza más en momentos puntuales como los períodos vacacionales o también en ámbitos concretos como pueden ser las zonas rurales en ese sentido nuestra enmienda es muy específica creemos que más allá de que se pueda

sí que es cierto que no solemos creemos que el cauce para atender y reflexionar sobre muchos aspectos o revisar aspectos como puede ser la atención primaria

de la situación de la atención primaria no nos opondremos y nos abstendremos en la petición del grupo eh bildu pero como digo para nosotros lo importante también en este momento es la revisión de dicha estrategia porque está claro que esta estrategia se ha quedado un tanto obsoleta como digo

del sistema y también cómo no para hacer frente a los retos del futuro no solo los

sino también retos que tenemos que abordar y que tenemos que hacer frente tras este año con todas las cuestiones

gracias señora presidenta buenos días señores y señoras parlamentarios nos vemos atrapados en el tiempo como en el día de la marmota

reforzar la atención primaria para adecuarla a los retos de una sociedad cada vez más envejecida

a estas alturas de la película después de años y años prometiendo plantear la creación de una ponencia casi suena a chiste

desde la política en colaboración con los expertos cuando debería ser justamente al revés

garanticemos que estos carezcan de afiliación política dejémosles hacer y después ya desde la política validemos aquello que estiman que sea de hacer ofrezcamos soporte a las medidas que planteen como necesarias pero no

el modelar desde la política siempre interesada lo que la ciencia estima que se ha de hacer es más los males de nuestra atención primaria son conocidos por todos

extremas dificultades para ampliar su cartera de servicios problemas para renovar las plantillas trabas para incorporar nuevos roles a nuestra enfermería

en definitiva desde vox creemos que no hacen falta ponencias pero tampoco revisar una estrategia que no parece dar resultados lo que hace falta es decisión y compromiso lo que nos hace falta son gestores abiertos a las opiniones y consideraciones

y necesitamos a responsables políticos dispuestos a hacer lo que hay que hacer

es evidente desde luego esa es nuestra opinión que la atención primaria como todo nuestro sistema

carencias tiene deficiencias muchas de las cuales la mayoría en realidad eran previas a la pandemia así lo hemos venido manifestando desde nuestro grupo y es verdad también que la pandemia

esas deficiencias hacerlas más evidentes más visibles y posiblemente también traer retos nuevos y cuestiones a modificar producto del nuevo escenario

y hay cuestiones que van a seguir afectando durante un tiempo al sistema sanitario y a la salud pública y algunas seguramente habrán venido para quedarse esos problemas especialmente los

algunos de modelo y estructurales podrían estar llamados a solucionarse partiendo de esa estrategia de atención primaria que conocimos hace dos años que en nuestra opinión así lo dijimos en su momento llegaba con mucho retraso

y con falta de concreción el propio gobierno vasco afirmaba en su momento cuando presentó la estrategia de atención primaria que esta estaba abierta a mejoras a reformulaciones

afirmaba cuando presentaron la estrategia en este parlamento que se trataba de un documento vivo dispuesto a incorporar aportaciones de los diferentes agentes

si a las cuestiones previas a la pandemia que generaban críticas o divergencias no solo en este parlamento por parte de diferentes grupos parlamentarios como puede ser el mío sino también por parte de los profesionales de la sanidad por parte de las asociaciones tanto de pacientes como de profesionales

el impacto que la pandemia ha traído a la salud y al propio sistema sanitario pues parece evidente en nuestra opinión la opinión de nuestro grupo parlamentario que es necesaria una nueva planificación o cuando menos una reflexión sobre

a realizar respecto de la atención primaria en euskadi el gobierno podría fingir que esas carencias y deficiencias son solo producto de la pandemia que son solo por tanto temporales pasajeras que una vez pasada esta habrán desaparecido por lo tanto tal vez no hacer nada o puede reconocer que están ahí

más allá del grado o la dimensión de las mismas que cada grupo o que el propio gobierno vasco esté dispuesto a reconocer nosotros obviamente somos partidarios

que hemos escuchado que existen por parte sobre todo de las y los profesionales que trabajan en la sanidad pública vasca así como por parte de distintos colectivos entre ellos colectivos de pacientes teniendo en cuenta todo esto este planteamiento que hacemos tenemos que decir que nos parece oportuna la propuesta de la señora

todas las cuestiones referidas a la atención primaria porque es verdad que en este parlamento

vamos a hablar vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones es verdad que en este parlamento tenemos la posibilidad de escuchar en la comisión de salud a expertos en sanidad

en salud pública a los propios trabajadores y trabajadoras de osakidetza a los profesionales

y que vamos a discutir iniciativas que traemos los grupos sin duda pero una ponencia como nos propone la señora

pensamos que puede permitirnos no funcionar a golpe de proposición no de ley en un momento tan delicado como este para la sanidad y para la salud pública nos puede permitir no solo la posibilidad de escuchar a quienes tienen algo que aportar algo que es fundamental sino también nos puede permitir discutir las diferencias que tengamos y que tenemos y que las conocemos fuera del rifirrafe de los debates del pleno por eso nosotros

de plantear ninguna enmienda a esta iniciativa nos parece una iniciativa

de combate contra el gobierno que no plantea más allá de lo que luego se diga en el discurso no plantea al menos la iniciativa en su texto no plantea una confrontación tampoco de modelos

permitir si se aprueba que el parlamento pueda jugar un papel específico respecto al debate sobre qué hay que

a la atención primaria en estos momentos en euskadi bien de qué pensamos nosotros que podemos hablar y debemos hablar en esa ponencia

que se aborden y sobre las que nos gustaría discutir cartera de servicios el gobierno siempre ha afirmado que la base no es discutible nosotros estamos de acuerdo no es discutible pero es ampliable de eso queremos y deberíamos discutir adecuación de la atención primaria a los entornos socioeconómicos es una cuestión

para mi grupo la coordinación sociosanitaria

que ha impactado de manera potente el impacto de las privatizaciones de las externalizaciones como quieran llamarlas los perfiles profesionales cuál es y qué tiene que hacer cada cual en la sanidad pública sanitarios

cómo hacemos atractivos los puestos en la atención primaria otra cuestión muy importante la separación

el modelo de sustituciones que tenemos la duplicación de consultas las cargas de trabajo

necesarias otro debate importantísimo estructurales respecto a funcionales y ligado a esto la financiación más allá de cifras concretas la financiación específica de la atención primaria y de la atención primaria en las diferentes

el consejo asesor de la atención primaria quién debe estar quién no debe estar los puntos de atención continuada hemos podido escuchar hace poco en la propia comisión de salud aquí hay

continuada que debe ser ya abordado y que no fue abordado en esa estrategia de atención primaria que en estos momentos tenemos el modelo organizativo

en la anterior legislatura la necesidad de que la atención primaria recupere

en un modelo que se ha convertido en nuestra opinión en excesivamente hospitalocentrista un análisis sobre este modelo que hemos escuchado a los agentes sociales que falta que nos ha hecho un análisis sobre el modelo de las osi que ya llevan un tiempo

esa integración de los diferentes niveles de nuestra sanidad pública o no se ha conseguido ahí a la hora de hablar de atención primaria

analizar esto y la importancia de la propia estrategia que se nos presentó

referencia de nuevo a él nos decía incluso que más allá más importante que la propia

era cómo la aplicamos cómo aplicamos esta estrategia bien todas estas cuestiones nos parecen importante e interesante que las pudiéramos abordar en esa ponencia que se nos propone y que nosotros por lo tanto vamos a apoyar

por supuesto referencia a la del partido popular que le pide al gobierno que revise la estrategia nosotros lógicamente no tenemos ningún inconveniente con que el gobierno revise la estrategia vamos a escuchar qué dicen los grupos

que hace falta algo más que pedirle que revisen la estrategia porque seguramente nos van a decir que ellos que el gobierno hace un continuo de revisión

estrategia por lo tanto nosotros nos vamos a abstener ante esa enmienda besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

llevamos de legislatura en el ámbito sanitario hay algunas cuestiones de las que hemos venido hablando con bastante

el proceso de vacunación pero en ese mismo ranking y también en los primeros puestos se encuentra la propia cuestión de la atención primaria yo les voy a ser sincero tampoco es que me haya parado a ver cuántas veces hemos hablado de la atención primaria

de las veces en las que ha ido como un punto del orden del día en alguna sesión además de las preguntas solicitudes de información documentada además de las comparecencias

no me falla cada vez que hemos tenido un debate de tipo sanitario

ha aparecido la cuestión de la atención primaria acompañada por cierto de las consiguientes apreciaciones afirmaciones y por supuesto propuestas

y yo creo que esto pone de manifiesto al menos dos cosas la primera es la importancia que todos los grupos parlamentarios le damos a la atención primaria pero también cualquiera de nosotros ha planteado aquí en numerosas ocasiones nuestra propia visión política de cómo abordar la atención primaria y fundamentalmente los retos que nos ha planteado la propia pandemia miren se podrá decir más alto pero no más claro los socialistas creemos que la atención primaria es un pilar esencial de nuestro sistema de salud

y es evidente que esta pandemia ha tenido importantes afecciones dentro de todos los sistemas sanitarios lo que sin duda alguna nos llama al refuerzo del papel y recursos de la atención primaria de salud que es en lo que estamos porque tal y como saben esta cuestión y en general el reforzamiento de nuestro

es algo que a los socialistas nos preocupa y nos ocupa y por eso también ocupa una parte importante del acuerdo de gobierno que suscribimos el pasado mes de septiembre

ya se han venido concretando en el propio marco estratégico dos mil veintiuno dos mil veinticuatro del departamento de salud así como con el consiguiente acompañamiento económico de los presupuestos que aprobamos el mes de diciembre bueno que aprobamos partido socialista y partido nacionalista vasco

algo que se les suele olvidar a algunos partidos cuando votan en contra de presupuestos que contienen por ejemplo medidas concretas para hacer frente y reforzar primaria porque es evidente y a nadie se le oculta que la pandemia de la covid diecinueve ha alterado la normalidad asistencial de todos los sistemas sanitarios

de determinados servicios y decir otra cosa sería simplemente querer negar la realidad porque como es lógico ningún sistema sanitario está pensado o estructurado

y esto hizo necesario que desde marzo del año pasado se vengan haciendo esfuerzos por los diferentes gobiernos

y ciudadanas para adoptar decisiones y para adaptarnos también a esas decisiones y en este parlamento se vino y se ha venido dando cuenta puntualmente de las numerosas y diversas actuaciones que se han adoptado para hacer frente a esta nueva realidad que como vemos y como siempre décimos

las conocen comités técnicos protocolos planes de contingencia refuerzos de plantilla adquisición de equipos formación apoyos a las estructuras de servicio pero en cualquier caso yo creo que esto es lo importante que se hayan hecho muchas cosas no significa que no haya nada por hacer yo creo que esa es la declaración más importante que se puede escuchar cuando se valora una situación como esta y en este mismo parlamento tanto por parte de la propia consejera como de los grupos partido socialista y partido nacionalista vasco han oído en más de una ocasión que hay un compromiso de mejora constante aprendido y en ese compromiso de mejora tal y como se recoge en el propio acuerdo de gobierno hay una apuesta absolutamente clara por la atención primaria y por seguir

cercanía para la ciudadanía pero yo creo que hay algo que no tenemos que olvidar este es también un objetivo de legislatura es decir más allá de las propias urgencias que nos haya podido plantear la covid hemeretzi y les decía que en eso estamos nosotros tenemos una hoja de ruta clara

de los que hemos hablado pero es que además no podemos perder de vista que esas medidas a adoptar también han sido fijadas por este parlamento y es que el pasado doce de noviembre

a lo que decía la grave situación de la atención primaria

para ver qué hay que hacer con la atención primaria cuando el doce de noviembre en su moción nos decía qué es lo que teníamos que hacer con la atención primaria sin ponencia ninguna y lo cierto doce de noviembre este parlamento aprobó sin ningún voto en contra las medidas que el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos presentamos para reforzar

tanto en relación con las urgencias que nos ha planteado la pandemia como con carácter general y pensando en el futuro es curioso que al no salir su moción

registrara un mes después la necesidad de esa ponencia que aunque la vemos hoy esto se registró en diciembre y lo cierto es que nosotros ya estamos actuando

se ha creado una nueva subdirección de atención primaria precisamente para potenciar el papel de la atención primaria en el conjunto de las osi se está ampliando y homogeneizando

diagnósticas estamos integrando de forma progresiva la fisioterapia en atención primaria y se apuesta por la investigación en atención primaria por la modernización la apertura de nuevos centros

ley de salud pública pero es que además hay un dato que tampoco se nos puede olvidar porque contamos con una estrategia de refuerzo

medidas concretas que todas ellas están en marcha y como saben esa estrategia fue el fruto precisamente del trabajo y reflexión con los agentes implicados

y miembros del consejo asesor con los que se mantiene un constante

siempre con el mismo objetivo que es reforzar este nivel asistencial absolutamente clave porque es indispensable adaptarse a las nuevas realidades para posibilitar que siga
mejorando el servicio a la sociedad vasca nada más y gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak

que la sesión de investidura fue testigo de que somos cada vez más

su premisa es incorrecta este modelo de gobernanza tiene más apoyos no solo a este modelo sino también respecto del suyo es bien fácil es cuestión de números ustedes tendrán otro modelo

pero el modelo del gobierno vasco tiene un aval claro y son ustedes los que no lo perciben porque mire la semana pasada la unión europea a través del índice europeo de calidad de gobierno ha certificado que el gobierno vasco es el mejor del estado y el décimo mejor de europa una valoración para la que han participado más de ciento veintinueve mil personas

sino en este caso además desea adecuar a los nuevos tiempos el modelo de atención primaria porque las deficiencias de la atención primaria y leo literalmente

empeorado la situación es precaria y está a punto de estallar

caóticos y alarmistas por parte de eh bildu por qué porque esta es la actitud que eh bildu ha mostrado durante toda la pandemia

orden y alternativa usted sabrá pero si usted cree que esta es la mejor manera de sacar réditos políticos en mi opinión esta no es la mejor manera

no creo que deban tratar de manipular la dialéctica para confundir a la ciudadanía o reforzar a quienes como ustedes piensan que cuanto peor mejor

está vacía no hay contenido detrás pueden seguir con la matraca no hay ningún problema durante los próximos tres años que nosotros aguantaremos y seguiremos trabajando

ahora bien van a agotar a la ciudadanía porque lo que el departamento de salud está gestionando es una realidad muy difícil derivada de la irrupción del covid en nuestras vidas porque eso es lo que se ha hecho irrumpir en nuestras vidas y alterarlas por completo aunque hay quien crea que nada ha cambiado y que todo hay que observarlo desde el mismo prisma mucha gente acude cada día la red de atención primaria

le voy a dar ciertos datos en una semana en el mes de abril se atendieron ochocientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta personas en atención primaria

y el incremento se corresponde básicamente con la actividad del centro no con la telefónica ciento noventa y cuatro mil pruebas pcr en atención primaria en el último mes

primaria no son precisamente datos que hablan de caos ni de estallido hablan de la fortaleza de un sistema que está haciendo un esfuerzo extraordinario

este escenario deja daños claro que sí no voy a ser yo quien lo diga obliga a esfuerzos adicionales a priorizar a retrasar otras actuaciones

en este tiempo el departamento de salud no ha dejado de prestar apoyo a la estructura del servicio de atención primaria ni a las personas que trabajan en ella la atención primaria es el eslabón fundamental de nuestro sistema es esencial con o sin pandemia

nos ha ratificado la importancia de una atención primaria fuerte ante las posibles epidemias y pandemias del futuro

de calidad y ahora con su clara apuesta por la atención primaria lo ratifica

es fundamental contar con las y los profesionales que trabajan en el día a día escucharles y poner sobre la mesa todos los puntos de vista también el de quienes trabajan en la administración en la gestión de la plantilla y en la distribución de los recursos análisis contraste reflexión

y por qué esta estrategia y no otra porque como les decía

una reflexión tanto a nivel de organizaciones de servicios de osakidetza de las osi como de asociaciones científicas

un trabajo compartido y liderado actualmente por la

el departamento de salud tiene por lo tanto estrategia está presentada explicada

lo que no quita para que pueda ser mejorada o actualizada como de hecho sucede

su atención primaria y hospitalaria sigan siendo referente por sus servicios su calidad y por la cualificación de sus profesionales en lo que nos ocupa la atención primaria esa estrategia tiene varios objetivos como primer objetivo y ya lo explicó la señora

como nivel asistencial de mayor proximidad a la ciudadanía para garantizar una mayor accesibilidad y evitar inequidades y desigualdades en salud

subsección perdón de atención primaria ampliando y homogeneizando la cartera de pruebas diagnosticadas que puede solicitar el personal médico de atención primaria

y todo ello acompañado de un incremento de la inversión para la modernización de los centros de atención primaria la actualización de los sistemas tecnológicos sin olvidar la innovación y el impulso a la investigación

y de enfermería incrementando sus plantillas para mejorar la asistencia sanitaria a la población

control y prevención ante nuevas enfermedades reforzando también las áreas administrativas y apostando por los nuevos perfiles funcionales y su formación la figura del farmacéutico de atención primaria y otra fórmula

comunitaria y como último y tercer objetivo la renovación de los centros

no vemos necesaria ni una ponencia ni una revisión de la estrategia porque el departamento de salud tiene un proyecto estructurado y comprometido con la ciudadanía un proyecto que se adapta a las nuevas realidades y que ha sido contrastado con todas esas personas que usted señora ubera cita en su propuesta me temo que llega tarde que ese camino que usted dice que hay que empezar a recorrer se lleva tiempo recorriendo

por cada partido o por el gobierno específicamente se propone una ponencia como la de un programa de recuperación

y nosotros junto con los socialistas vascos propusimos la ponencia para trabajarla en el seno del parlamento pero sobre salud pública

independientemente de los acuerdos puntuales que podamos alcanzar entre los diferentes grupos políticos para mejorar dicho modelo pero no para cambiarlo beste barik eskerrik asko

elkarlan hori bideratzeko y no se trata de decir sino que se trata de hacer hacer hacer hacer y no voy a decir que no estén haciendo nada pero es un dato objetivo es un dato objetivo que la situación está

sí voy a intervenir porque creo que aunque no hayamos hecho enmienda y aunque la iniciativa sea

más amplio que un rifirrafe entre el partido nacionalista vasco y eh bildu al respecto de sus respectivas estrategias de confrontación

más allá de que esto pues bueno suena repetitivo y lo digamos todos

porque veo una he visto una contradicción que sí que no esperaba en este caso por parte del pnv por la señora berrojalbiz cuando nos dice creo que al final de su intervención

ni ponencia ni revisión de la estrategia de atención primaria y en otro momento de su intervención pues sí me ha parecido entenderle

pero sí la estrategia necesita ser revisada

me parecía insuficiente porque que ustedes vayan revisando su estrategia pues estupendo pero en este parlamento lo interesante es que esa estrategia

revisar con los puntos de vista de los diferentes grupos parlamentarios y con algo que posibilita la ponencia que es con el punto de vista de otros agentes de profesionales en especial de los profesionales

los grupos que sostienen al gobierno que el gobierno cuenta con ellos

incluso cuando vinieron a comparecer para darnos su visión de la propia estrategia de atención primaria decirnos que no se cuenta con ellos

contradicciones reseñables y además una consecuencia práctica de eso pues son las continuas el continuo estado de movilización

sino desde hace años desde hace años y como he dicho en otras ocasiones no solo los sindicatos de clase sino sindicatos por así llamarlos

etcétera y con reivindicaciones constantes respecto a muchas materias de sanidad pública pero también

a la atención primaria a la estrategia de atención primaria y sobre aquello a lo que hacía referencia antes que nos decía el propio gobierno cuando trajo esa estrategia que incluso más allá de la propia estrategia lo importante es cómo se aplica y cómo se está aplicando

tener en este parlamento la posibilidad de esa ponencia donde revisemos todo lo anterior y revisemos también ese impacto en la atención primaria pues desde luego a nosotros no nos parece

yo les diría una cosa en mi grupo parlamentario cuando negoció los últimos presupuestos con ustedes que no llegamos finalmente a un acuerdo una de las cuestiones que planteábamos

si ustedes quieren respaldo para los presupuestos en esta materia y en otras trabajen con los grupos de la oposición durante todo el año las iniciativas las propuestas porque si no llegamos al momento de los presupuestos y esto es un mercadillo le pongo diez aquí están ustedes contentos o no bueno hoy ustedes coartan con su voto una iniciativa que no es nuestra

donde poder abordar cuestiones concretas que luego tienen su reflejo presupuestario por lo tanto bueno

a mantenernos en la posición sí hemos dicho que la iniciativa nos parece oportuna la vamos a votar la enmienda del partido popular por lo expuesto anteriormente

que se plantea sobre todo no por parte del partido socialista en este caso por parte del partido nacionalista vasco donde no he oído muchos argumentos de peso más allá

con el grupo proponente si lo llego a saber sí hago una enmienda el resultado hubiera sido el mismo por lo tanto

la sensación igual les ha pasado os ha pasado alguna vez de que sabes que cuando quedas para hablar con alguien siempre vas a acabar discutiendo y aun así sigues quedando y

de que en estos temas de salud con eh bildu pasa eso

se nos plantea o se nos pone una mochila

que sostenemos al gobierno porque nos dice no es que ustedes no van a apoyar esta ponencia que es absolutamente necesaria decía el representante de elkarrekin podemos que vamos a coartar yo no voy a coartar absolutamente nada

para que el doce de noviembre eh bildu trajera aquí una moción con siete puntos

sin ponencia ninguna eh bildu tenía claro qué es lo que había que hacer con la atención primaria que se vote no salga

la enmienda del grupo socialista el grupo nacionalistas vascos que como les suele gustar

era bastante larga sin ningún voto en contra de la cámara estableciendo qué es lo que tenemos que hacer con la atención primaria y como no ha salido la de eh bildu menos de un mes después nos plantea que ahora sí hace falta una ponencia qué es lo que ha cambiado porque nos dice es que lo que hay que hacer

porque es un órgano para pensar para hablar pero no para hacer no es que hoy estemos diciendo

y no hay que tocar absolutamente nada no lo que décimos es la atención primaria al igual que el resto de la sanidad pública hay un compromiso de mejora constante

se aprobó esta enmienda del grupo socialista y del grupo nacionalista vasco sin ningún voto en contra de la cámara

tanto en lo relativo a las urgencias que nos ha planteado la covid diecinueve como con la atención primaria como objetivo de legislatura es decir más allá pensando en el futuro y lo vuelvo a decir sin ningún voto en contra de esta cámara entonces yo no acepto esa mochila no es o lo mío o el caos no es o lo mío o la nada es que en este parlamento hemos hablado de atención primaria todos los días

es que hemos debatido mociones sobre atención primaria y hay acuerdos de este parlamento sobre la atención primaria decía algún interviniente en el primer turno

las ponencias no son resolutivas usted dice hay que hacer una ponencia no hace

una ponencia podrá darle vueltas a un tema durante mucho tiempo y establecer y yo no voy a desvalorar la labor

que se necesita hacer y luego incluso tenemos que decir que esa estrategia que se aprobó aquí en el año dos mil diecinueve que está en constante revisión en constante revisión y además

con el propio sector ya establece muchos de los puntos que usted plantea para la ponencia porque nos dice no que haga creo recordar que era

en esa estrategia ya está recogido el análisis de las últimas décadas

eso ya está recogido entonces evidentemente

y el compromiso que tenemos desde el grupo socialista desde el grupo nacionalista vasco lo explicará la señora berrojalbiz como miembros que sostenemos a este gobierno está perfectamente explicitado en nuestro acuerdo de gobierno

como puede ser la estrategia fijada por el departamento como son los propios presupuestos lo vuelvo a decir los presupuestos es que nosotros hacemos y eso es lo que yo quiero dejar claro hoy con nuestro voto en contra

que no haya que hacer nada no todo lo contrario decimos que estamos haciendo que estamos comprometidos con ello que estamos abiertos a las aportaciones que sean necesarias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

popular taldearen ekimenari eta eh bilduren ponentziari dice usted que yo con argumentos de poco peso señor hernández

mire salvo que usted considere que una estrategia fijada por profesionales y gestores de salud

argumentos de poco peso sin que usted contra argumente mis argumentos supuestamente de poco peso usted me dirá mensajes vacíos pero poco argumentados

usted conoce bien la estrategia para reforzar la atención primaria

y usted sabe perfectamente que el departamento de salud el gobierno vasco está impulsando y poniendo en marcha medidas concretas

nuevas medidas organizativas y esto es autoexigencia no autocomplacencia hechos y pasos adelante señora ubera

porque creemos firmemente en su fortaleza y capacidad de respuesta no parece muy prudente intentar crear una falsa alarma en la sociedad en estos momentos tan delicados que extrapola en sus casos particulares de vaya usted a saber de quién

que sigue por supuesto en un estudio de percepción de la ciudadanía vasca sobre diversos aspectos del covid el cuarenta y seis por ciento señaló que la respuesta del sistema sanitario de euskadi

como mucho son con el dos por ciento que dijo en esa encuesta que todo era peor volviendo a la encuesta el setenta y cuatro por ciento de los ciudadanos vascos piensa que el gobierno vasco está teniendo una atención buena con pacientes covid y el dieciséis por ciento buena

buena o muy buena y la nota media sacó del siete coma seis notable si usted se queda solo con el cinco por ciento que piensa que es mala me parece estupendo pero no vuelva a venir aquí a hablar en nombre de la ciudadanía señora ubera son ustedes los que realmente trasladan a la ciudadanía la sensación de un servicio público

y eso además de falso es absolutamente irresponsable

ahora la ayuda de todos y todas es más necesario que nunca elkarlana da bidea eta konfrontazioa

beharrezkoa y por terminar no quería finalizar mi intervención sin trasladar mi agradecimiento mi cercanía y todo el apoyo a los miles de profesionales que trabajan en nuestro sistema de salud

muy especialmente a quienes han de atender directa y personalmente a estos y estas enfermas tratando además de mantener el resto de la actividad asistencial con normalidad

y gracias a la consejera que hace justo una semana recibió el respaldo de este parlamento para continuar ejerciendo su gran trabajo con la profesionalidad y el empeño demostrado

migranteak baina goazen datuetara euskadi se encuentra entre las comunidades autónomas más desiguales del estado a finales de dos mil diecinueve casi trescientos cuarenta mil personas estaban en riesgo de pobreza y exclusión social

el treinta por ciento de ellos hogares monomarentales en lo que llevamos de año dos mil veintiuno han fallecido cuatro personas en la calle pior fátima víctor yolanda capitales como bilbao han visto desbordadas su oferta en septiembre del año pasado había setecientos diecisiete personas

era de seiscientos treinta y seis es decir no cubrían todas las necesidades respecto a vivienda

y dos de cada tres personas que la solicitan no disponen de respaldo económico suficiente para afrontar esta necesidad

como señalan diferentes organizaciones muchas personas terminan sufriendo sinhogarismo por el hecho de ser quien son por no responder al mandato heterosexual a nivel estatal

por ciento de las personas trans han tenido que vivir en la calle o en recursos de emergencia

han experimentado sinhogarismo con estas cifras

en el avance de derechos y en el reconocimiento de todas las identidades estamos ahondando en la violencia que desde las instituciones ejercemos contra personas

un compromiso inequívoco en su protección y garantía de derechos teníamos una foto del sinhogarismo antes de la pandemia y una estrategia que por cierto ya criticamos en su momento por no contar con metas claras de indicadores de evaluación por no contar con un presupuesto por dejar a la voluntariedad de los ayuntamientos adherirse o no que difícilmente podía estar preparada para dar respuestas eficaces a una

ahora tenemos otra foto general bastante peor si cabe los datos decían que ya iba en aumento pero por el impacto de la pandemia se ha agravado el número de personas en situación de calle la exclusión residencial grave

y el que llegará el impacto de la salud mental ya presente entre nosotras pero más acusada en las personas que están en riesgo de exclusión social todo esto también requería de fotos precisas de cuál es la situación real pero no las encontramos

porque no las han hecho así que por eso traemos este tema y por eso consideramos urgente la aprobación de esta moción porque vemos cómo empeoran las condiciones de vida de la ciudadanía vasca por la brecha de la desigualdad que ya vemos en nuestras calles

los perfiles de población en situación de sinhogarismo y porque vemos cómo las políticas están generando

de niños y niñas víctimas de políticas de seguridad en las fronteras y de criminalización de la migración lo que está pasando en ceuta como ya pasó en moria como pasa en canarias como pasa en irun son estructuras

y a la adolescencia a la exclusión social a vivir en la calle y siempre con la sospecha de una sociedad que desconfía de ellos y ellas

pero lo que provoca de verdad es inseguridad en sus vidas y en el tránsito de sus vidas hacia una vida adulta plena y digna

están mitigando los efectos del parón social y económico pero es necesario renovar el proyecto de políticas sociales para euskadi es necesario plantear bases sobre las que asentar

que no ha tenido el desarrollo esperado y en ese sentido es necesario adoptar acuerdos ya y desde mi grupo parlamentario no queremos quedarnos cruzados de brazos

porque vamos a encontrarnos sin capacidad para desarrollar políticas que de verdad mejoren de forma real la vida de las personas especialmente

los puntos que señalamos en nuestra moción son acciones concretas acciones que responden con una mirada integral a las necesidades más urgentes que ha destapado la pandemia y que son clave fundamental para proteger de las personas sin hogar acciones desde las que elkarrekin podemos izquierda unida creemos que es necesario

inequívoca de guiar la atención del sinhogarismo desde un enfoque de derechos de los derechos fundamentales que todas las personas deberíamos tener

por eso vemos la necesidad de un servicio de coordinación la pandemia ha demostrado que la estrategia no sirve igual en todas las administraciones que voluntariamente se adhirieron a ella

liderada por gobierno vasco la que puede determinar la capacidad de respuesta rápida y urgente al resto de administraciones y como ejemplos de lo que no puede pasar

con menores a su cargo que dormía en un coche cuando el confinamiento es necesario que una figura como el ararteko tenga que intervenir en un caso así y no sea la administración local con una estrategia que tenemos en marcha que ataje

o también otro ejemplo de lo que no puede pasar es lo que ocurre con las viviendas comunitarias gestionadas por el tercer sector donde lanbide

independientemente de las personas que residan en el inmueble y el ararteko también se ha tenido que pronunciar a este respecto

para evitar políticas que excluyan y trazar una hoja de ruta común porque si no avanzan todas las administraciones hacia el mismo horizonte

eso es una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia en definitiva un servicio de coordinación

con personal especializado y con capacidad para la inspección de las actuaciones que se llevan a cabo otro punto

un compromiso de mantenimiento de programas extraordinarios así como el refuerzo de los servicios sociales municipales

porque queremos que programas como lehen urratsak no desaparezcan cuando desaparezca el fondo covid ya lo propusimos en las enmiendas de presupuesto

que este parlamento puede acordar y guiar la acción del gobierno en consolidar dichos programas y asegurar su continuidad más allá del estado de alarma

y así nos hemos visto que en el proyecto de ley covid no se hacía ninguna mención al tema del sinhogarismo y también nos lo demuestra el hecho de que en estos presupuestos hayan sido diseñados con programas temporales

de manera increíble en los momentos más duros de la pandemia compartíamos y compartimos la inquietud y la propuesta que nos hacía euskal herria bildu en su enmienda del refuerzo de los servicios sociales municipales pero nosotras insistimos que no pueden ser la única ventanilla

las necesidades de la exclusión social y de nuestras vecinas y vecinos debe de haber un reparto de tareas y responsabilidades de todas las administraciones una colaboración y coordinación con el tercer sector y una garantía de enfoques interseccionales en la atención

en exclusión social en tercer lugar quiero destacar que necesitamos esta moción porque necesitamos una estrategia integral de atención

esta vez porque no queremos repetir errores de la estrategia actual queremos políticas públicas vinculantes aterrizadas que se adecuen al impacto de la pandemia

que incluyan la atención especializada a las nuevas necesidades detectadas

los servicios sociales y el tercer sector que partan de una evaluación real de cuáles están siendo los mecanismos de coordinación más eficaces cuáles tienen que ser los lenguajes comunes de unos sistemas y otros y cómo deben entenderse para no echar por tierra el trabajo que se ha realizado desde uno y otro ámbito

empadronarse es un mecanismo necesario para acceder a derechos básicos regulado por ley y del que no hay un seguimiento o una evaluación

no se implementa ni sigue unos criterios de actuación comunes en todas las administraciones locales y esto es un problema y hay que exigirlo y velar por que se cumpla

en quinto lugar y por último es importante aprobar esta moción porque instamos

por qué porque se han olvidado de ellos y de ellas

sino de trazar estrategias de colaboración estrecha y efectiva con los servicios que utilizan estas personas los alojamientos la alimentación las rutas de calle centros de día así como todas las implicadas vivienda servicios sociales las entidades del tercer sector que trabajan de manera directa con esta población y debería plantearse un sistema flexible que permita varias oportunidades de fácil acceso para recibir la vacuna para finalizar

hemos llegado a un acuerdo con euskal herria bildu y con el resto no ha podido ser a pesar de

en algunos podíamos estar de acuerdo y en otros no no ha podido ser los puntos de esta moción no quieren cerrar la puerta a seguir construyendo estrategias a medio

si bien la mayoría de nuestras propuestas abordan necesidades más urgentes

porque es necesario la dimensión del sinhogarismo en euskadi

la infravivienda la perspectiva de género que aumenta el número de sinhogarismo oculto y que solo durante la pandemia se ha hecho visible quiero acabar con una idea del experto en planificación de políticas públicas sociales y asesor del ayuntamiento de barcelona

de la ley covid y que sobre el sinhogarismo y la crisis de la covid decía nada debe volver a ser como antes

en los próximos meses los servicios sociales y otras entidades van a desbordarse tratando de parar una hemorragia con tiritas

tiene vocación preventiva y por ello les invito a que entre todas seamos capaces de abordar el tema como se merece y no ponerle más tiritas
a un tema tan doloroso eskerrik asko eskerrik asko

tienen derechos pero también tienen obligaciones la diferencia entre ustedes y nosotros señores de la izquierda es que mientras ustedes ponen el foco únicamente en los derechos

y este apunte no es baladí los derechos no caen del cielo hay que luchar por conseguirlos pero también por mantenerlos un derecho implica responsabilidad supone obligaciones que si no se cumplen hace que nazca la injusticia

las clases medias para tener derechos debemos cumplir con cientos y cientos de obligaciones muchos otros no

diario le damos la razón en un asunto sobre la gente sin hogar no se puede generalizar

intento de hacer afirmaciones rotundas suele ser un error

de hecho lo estamos con que la situación de españa y de nuestra autonomía es especialmente delicada hemos visto retroceder a la clase media hasta niveles de pobreza real todos recordamos el desahucio del dueño del escarmiento

que ha pasado de hablar de las condiciones materiales de la sociedad para pasar a defender derechos universales sin tener en cuenta los primeros su plan de gobierno consiste en masacrar sistemáticamente a las clases medias para igualar por debajo siempre a todos en una pobreza que nos haga depender de ustedes y sus migajas en vox décimos no a sus planes delirantes a esas ensoñaciones que nos dirigen poco a poco a la ruina nosotros proponemos un plan de choque para rescatar a las clases medias a las clases trabajadoras

y es que nosotros creemos que nuestra labor la de esta cámara debe ser rescatarles devolverles la riqueza y eso solo se puede lograr reactivando la economía creando empleo bajando los impuestos y ayudando por supuesto a los que han perdido su empleo para que quede claro nosotros no nos vamos a andar por las ramas
ayudemos a todas las personas que lo necesiten pero por supuesto los españoles primero gracias eskerrik asko martínez andrea

legebiltzarrean sin duda la situación de las personas sin hogar es una situación delicada

por la pandemia y la crisis sanitaria que estamos padeciendo

esta iniciativa original del grupo podemos esta moción hay dos enmiendas de transacción una en la que hemos participado con los grupos que apoyan al gobierno y por lo tanto es la posición que voy a defender agradezco al señor díez y a la señora sánchez también su disponibilidad a acordar sobre dos textos

bastante compartida en los puntos esenciales sobre esta cuestión en relación a la enmienda

podemos y el grupo proponente y eh bildu

no a favor porque obviamente tenemos nuestro texto de transacción sobre la propuesta original

sin hogar están en una situación de especial vulnerabilidad estructural pero sí que es cierto que

por la pandemia y en ese sentido yo creo que estas circunstancias también tienen que ser

son personas que principalmente tienen necesidades de vivienda y el objetivo tiene que ser la inclusión desde nuestro punto de vista la integración social y laboral por ello también no creo que en un primer momento a estas personas hay que darles la atención que merecen y cubrir las necesidades más inminentes que puedan tener como son las necesidades de vivienda

seguir su integración como decía tenemos vigente una estrategia vasca para personas sin hogar para los años dos mil dieciocho dos mil veintiuno y hace hincapié en la vivienda en la prevención de la exclusión

y en la intervención temprana con distintos programas la atención como he señalado se centra en el acceso a la vivienda que es el punto en común que presentan todas estas personas tiene un enfoque preventivo y un carácter multidimensional como no podía ser de otra manera nosotros

hemos considerado oportuno enmendar esta iniciativa proponiendo un análisis de estas personas de la situación de estas personas pero evaluar esta estrategia cuando obviamente corresponda y elaborar una nueva estrategia

es los puntos en los que se ha acordado los términos en los que se ha acordado la enmienda de transacción
y en ese sentido pues es el texto obviamente que vamos a apoyar el que hemos suscrito besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

cuando hablamos de las respuestas que ofrecemos a estas vivencias vitales tan extremas y escuchando a la consejera en la interpelación que motiva esta moción pienso que ella no lo hizo

se ha sido capaz de articular para que las personas sin techo puedan hacer efectivos sus derechos sobre todo en esta época de pandemia trató de alimentar un relato de respuesta coordinada territorialmente equilibrada suficiente satisfactoria que yo creo que tiene poco que ver con lo que ha pasado y creo que no es asumible desde posiciones decididas y comprometidas con la erradicación del sinhogarismo con esto no quiero decir con esto no quiero decir que no se hayan dado respuestas porque se dieron sobre todo en la primera ola con la articulación de programas como aterpea o posteriormente

que desde luego hay que poner en valor y nosotros los ponemos en valor como hay que poner en valor el esfuerzo decidido por ayuntamientos como el de renteria

han creado plazas nuevas han habilitado nuevos espacios

o para que no me digan que tiro para casa

iniciativas que recientemente se han puesto se han anunciado en el ayuntamiento de donostia

en colaboración con bares o restaurantes o las activadas por grupos de vecinos y vecinas como los de la parte vieja donostiarra que llevan cinco meses ofreciendo cenas a las personas en calle que no tienen sitio en los albergues porque no

pero hemos sufrido cuatro olas hemos seguido tirando de esas primeras respuestas puestas en marcha articulando respuestas puntuales

pero la demanda sigue creciendo y no hay una respuesta y menos suficiente y coordinada y los agentes sociales con los que la consejera artolazabal nos invitaba a hablar

nuevos servicios y señala además que la respuesta no tiene que venir solo desde los servicios sociales que es un problema que va más allá

decía ella les advertimos pero no nos hicieron caso se quejaba la consejera artolazabal baina kontua da

honek hartu dituela eta beste batzuk etxerik gabeko estrategiarekin atxikituta dauden udalek hartu dituztela y nosotras también lo advertimos y tampoco nos hicieron caso

con estar dormido o sin deambular es suficiente como dijo el alcalde de bilbao o

con el desalojo del infierno en donostia ambas decisiones tomadas por ayuntamientos adheridos a la estrategia de personas sin hogar

baina oso bestelako errealitatea erakusten dute datuek la estrategia no parece haber sido eficaz sino ni capaz

que además de evaluar haya que reparar y un informe realizado por el sis en dos mil diecinueve apuntaba que seis años después de que entrara

los derechos digamos recogidos en el decreto de cartera de servicios sociales y doce después de la aprobación de la ley decía que en el ámbito de los servicios sociales para la inclusión se han puesto de manifiesto algunas dificultades importantes entre ellas la carencia de un modelo común de intervención desequilibrio

dificultades de limitación de las funciones entre los diferentes niveles de atención ausencia de fórmulas estables de coordinación y cogestión y la falta de articulación

y debilidades se han puesto de manifiesto y se han agravado sobre todo a la hora de atender a personas sin hogar en este momento de pandemia

producido una falta de plazas por la limitación de los aforos en los centros o con las nuevas formas cuando ha habido que buscar nuevas formas de intervención para nuevas para los nuevos perfiles porque cada vez hay que ya no transita sino que decide quedarse por periodos largos en un municipio o cuando se producen situaciones de desamparo o peligro vinculadas a enfermedades mentales o discapacidad psíquicas que deben ser tratadas

y que son insostenibles para los servicios sociales honen guztiaren aurrean etxegabetasunaren fenomeno eta berarekin erlazionatutako bizipen pertsonalen amaierarekin

sí gracias muchas gracias presidenta llevamos más de un año sufriendo los efectos de la pandemia del covid hemeretzi y somos conscientes que los efectos de la misma los hemos sufrido toda la ciudadanía

de lo que eso puede implicar sobre personas sin hogar a finales de la anterior legislatura desde dos mil dieciocho contamos con la estrategia vasca

y es importante adoptar medidas que sirvan de forma efectiva para reducir el sinhogarismo debiendo

necesariamente sobre situaciones que han podido producirse la estrategia vasca para personas

constituye y ha constituido un instrumento adecuado para mejorar el sistema

y no solo desde los servicios sociales sino también hace referencia a la vivienda y contribuyendo con esto a la doble vía de la atención

basándose en una planificación centrada en la persona y en la vivienda con el fin de conseguir reducir el número de personas sin hogar ya señalaba

la consejera de igualdad políticas sociales y justicia beatriz artolazabal que es una estrategia integral

situadas en la exclusión residencial orientada a la mejora de la calidad de los servicios que prestan en alojamientos temporales de acogida diurna y nocturna así como

y dicha estrategia se elaboró por un grupo de trabajo interinstitucional creado para este fin

debiendo de destacar el importante trabajo de colaboración que realizó el gobierno vasco junto al resto de administraciones públicas y entidades del tercer sector social

el gobierno vasco consciente de la incidencia que podría tener el covid diecinueve sobre las personas sin hogar no dudó en adoptar diferentes medidas para paliar las consecuencias que pudieran ocasionarse se ha llevado a cabo

en la mesa de diálogo social para las personas sin hogar y sin recursos se creó el fondo

dotado de diez millónes de euros que permitía diseñar ocho programas

también atendieron a personas sin hogar que vivían en la calle o bien

se vieron en la calle como consecuencia de los efectos de la pandemia

habilitaba lugares para acoger a personas en situación de sinhogarismo en las tres capitales atendiendo a mil seiscientos treinta y cinco personas se ha contado con

sarea indartzen que es una última red para cobertura de las necesidades básicas de personas y familias con falta de recursos

y personas sin hogar se beneficiaron de la misma se contó también con el programa heldu

que atendió a ochocientos treinta y dos personas en el año dos mil veinte muchas de ellas también personas sin hogar y hay que hacer referencia también a lehen que incorpora la puesta en marcha de itinerarios desde los recursos de alojamiento acogimiento y acompañamiento de las personas sin hogar que fueron acogidas

y durante el año dos mil veinte las ocho entidades que intervienen en el programa

también durante el año dos mil veintiuno se han seguido manteniendo dichos programas tanto en aspectos habitacionales como de cobertura de necesidades básicas y atención

muy enfocados a las personas sin hogar contando con un presupuesto de nueve millónes de euros y por último esta experiencia

personas sin hogar a la próxima estrategia que se vaya a elaborar el confinamiento ha permitido poder llegar a todas las personas sin hogar poderles ofrecer una alternativa habitacional

también setecientos personas aceptaron este programa y siguen siendo

de acogerse a un proceso más continuado de entidades sociales y no podemos olvidar

voluntariamente a la ayuda que se les ofrece y en todo momento se ha contado con la colaboración del tercer sector

adoptado medidas antes de la pandemia y desde el inicio de la pandemia hasta ahora no podemos hablar señora gonzález como usted

no se puede hablar de una fobia a la pobreza nada más lejos de la realidad el gobierno vasco ha puesto en marcha numerosas medidas dirigidas a personas sin hogar la actual estrategia vasca de personas sin hogar

y el departamento de igualdad políticas sociales y justicia ya manifestó su deseo de incorporar toda esta experiencia que se ha llevado a cabo durante todo el proceso de la pandemia a la misma

de la misma y de la próxima estrategia vasca de personas sin hogar hemos intentado llegar a un acuerdo con diferentes grupos de la cámara al final hemos cerrado un acuerdo con el popular y agradezco a la señora garrido el esfuerzo para que hayamos llegado los tres grupos el grupo nacionalista el grupo socialista el grupo popular ciudadanos a la enmienda transaccional

podemos es porque solicitaban la creación de esta comisión pero es que ya existe una comisión de coordinación creada y que ha venido además trabajando a lo largo de la pandemia

era el tenerlos en cuenta a este colectivo dentro de la campaña de vacunación y nosotros consideramos que

general de vacunación acordada a nivel estatal y acordada también con las diferentes comunidades autónomas pero conscientes además de la dificultad que podía tener este sector en nuestra comunidad autónoma el gobierno vasco junto con diputaciones y con eudel se ha establecido un acuerdo de cómo llevarla a cabo

sector en cuanto a cómo mejorar para llegar al mayor número de personas sin hogar dentro de la campaña de vacunación y especialmente para aquellas

dirección sociosanitaria es decir se tiene en cuenta

que puede tener unas dificultades y se están buscando soluciones para poder llegar al mayor número

posibles dentro de la campaña de vacunación para las personas sin hogar y desde luego no hemos intentado ningún tipo de acuerdo no está ahora la señora martínez en el hemiciclo con el grupo vox porque desde luego proponía

que pedía que se paralizaran todas las partidas destinadas a ayudas de trabajadores en situaciones de desempleo y de erte por culpa de la covid vamos a ver si lo que están pidiendo es que se paralicen precisamente esas ayudas lo que va a conseguir

es que puedan existir más personas con dificultades y precisamente incrementar las personas que pueden estar en situación de exclusión y poder tener problemas de vivienda la señora martínez en el punto segundo decía

de la ciudadanía pues si la forma de preocuparse por los problemas de la ciudadanía es esta vamos bien afortunadamente nosotros realizamos otro tipo de políticas precisamente dirigidas a enfocar correctamente

con los que se enfrentan las personas sin hogar y por eso vamos a apoyar la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo nacionalista vasco y con el grupo popular ciudadanos sobre la que hablaré

pandemia heldu zitzaigunean y con respecto a la primera

pues nosotros consideramos que es de justicia reconocer que el gobierno estaba trabajando cuando llegó la pandemia creemos que es de justicia decir que cuando la pandemia llegó

unas líneas claras de actuación estaba aprobada la estrategia vasca para personas sin hogar dos mil dieciocho dos mil veintiuno una estrategia cuya principal característica era la prevención estaba destinada a garantizar una adecuada distribución de los recursos de una manera territorial su objetivo era generar un modelo de atención

y el gobierno ya había preparado un camino con respecto al segundo factor

creemos que el gobierno respondió rápido y respondió bien lo primero que hizo fue activar la comisión de exclusión una comisión interinstitucional e interdepartamental en la que participaron diferentes departamentos del gobierno políticas sociales vivienda salud y una comisión que se compuso por el gobierno vasco las diputaciones forales

el tercer sector social también creó el fondo inor atzean utzi gabe diez millónes de euros ocho programas

atendidas de todos estos programas que se pusieron en marcha cuatro dieron respuesta concreta a la problemática

el programa aterpeak estaba destinado a habilitar lugares para poder acoger a estas personas en situación de sinhogarismo en las tres capitales vascas

otro programa el programa azken sarea indartzen estaba dirigido

personas que no podían acceder por determinadas condiciones ni a las ayudas de emergencia social

otro programa el programa erdu destinado a la intervención en proximidad a personas con adicciones el año pasado atendió a ochocientos treinta y dos personas y finalmente creemos que cabe destacar

un programa que tenía como objetivo poner en marcha itinerarios

a la inclusión sociolaboral de las personas en situación de sinhogarismo intervinieron ocho entidades

personas y todas estas medidas que me consta que ya conocen porque no es la primera vez que se enumeran en esta tribuna eta nireak ere batzuk aipatu dituelako son ejemplos de cómo el gobierno vasco dio respuesta a la pandemia y a la problemática de las personas en situación de sinhogarismo en este país en euskadi son ejemplos de políticas concretas que sirven para mejorar

ejemplos de anticipación y respuesta eso es hacer política

trabajar para prevenir insistir para mejorar persistir cuando llegan situaciones complicadas

tomar decisiones que afecten directamente a la vida de las personas y estas decisiones afectaron positivamente a estas personas porque no podemos olvidar que las decisiones que toman las administraciones pueden afectar positivamente o negativamente y a las personas en situación

otras decisiones de otras administraciones también les afectaron y no precisamente positivamente

a cerrar pensiones y esa decisión se tomó a sabiendas de la situación de riesgo que podía provocar que se tomó la decisión a sabiendas es porque nos consta que el gobierno vasco ya avisó de la situación que podían provocar y no solo el gobierno vasco también lo advirtieron las

pero esas decisiones se tomaron y no es cuestión de echar la culpa a nadie se tomaron y tuvieron sus consecuencias y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es

afectaron menos se trata de ver cómo se puede ayudar a la gente en definitiva es eso trabajar

en situación de sinhogarismo por lo tanto hemos visto que euskadi previno y euskadi reaccionó

y como en otros aspectos tenemos que considerarla una oportunidad

es tiempo de demostrar que hemos aprendido de todas esas cosas

otra oportunidad es que muchas de esas personas han confiado por primera vez en las instituciones pues todo esto es un activo que

estrategia vasca para personas sin hogar y nosotros estamos convencidos de que el gobierno vasco va a ser capaz de aplicar todo este conocimiento y todos estos activos que ha recogido

que les acabo de explicar por lo que nosotros hemos presentado nuestra enmienda originaria y después por lo que hemos alcanzado un acuerdo con la representante

que la enmienda transaccional que van a apoyar otros grupos y también la vamos a apoyar porque entendemos

en el que se encuentran y también porque creemos que es una enmienda más constructiva y también porque hay algunos puntos del texto original que a lo mejor no compartimos

de valorar en definitiva que vamos a apoyar nuestra enmienda porque la consideramos

a mí desde luego la enmienda a la que han llegado al acuerdo al que han llegado

ni siquiera valiente porque realmente a la enmienda que han llegado es hacer lo que tienen que hacer

nosotras sí somos conscientes que nosotras traíamos una moción que no planteaba

a toda la causa estructural del sinhogarismo pero sí articulaba unas propuestas muy concretas muy propositivas y muy aterrizadas

decía la señora sánchez es que la campaña de vacunación todas lo sabemos pero dónde están las personas sin hogar

en la campaña vasca dónde están decía también la señora sánchez que sí que han contado con el tercer sector es que es normal porque el tercer sector es el que está a pie de calle con las personas

una gran carga de responsabilidad sobre esa atención una carga que debería estar asumiendo el gobierno vasco y qué ha hecho tensionar

municipales a las trabajadoras sociales y al tercer sector para dar esa respuesta y no pedíamos una comisión

un servicio de coordinación entre todo esto

mensajes a la ciudadanía de que nos cuidemos entre todas y eso para nosotras es eludir la responsabilidad institucional que tiene

cuando se permite eso que los servicios sociales estén saturados

que el tercer sector sea el que dé todo ese apoyo directo continuamente oíamos responsabilidad individual pero se ignora la capacidad de respuesta individual en el autocuidado

cuando no se tiene un techo debajo del que dormir cuando no se tiene acceso al agua potable porque se cierran las fuentes o cuando tienes unos niveles de ansiedad crónicos como le pasa a muchísima de la gente que vive en la calle exigir responsabilidad individual y además exigirla desde el control

injusto e inhumano y es vaciar de contenido la responsabilidad pública que tenemos en cuanto a las respuestas

desde los diferentes grupos hay que hacer una verdadera labor de investigación para sacar claridad de las respuestas que nos dan a estos temas

y además que bueno pues se remiten a pasado

y que la respuesta es eso que aguanten los servicios sociales de base que tire por todo el tercer sector y

evaluación ni seguimiento a los ayuntamientos por ese voluntarismo y esa falta de presupuesto entre otras muchas cosas

ante la enmienda que presentaba el grupo de vox ante los discursos de

racismo xenofobia aporofobia elkarrekin podemos izquierda unida mi grupo parlamentario apuesta por el blindaje

para todas las personas y para finalizar quiero agradecer al tercer sector a las profesionales que están en los servicios sociales de base

que desde la empatía y el compromiso con el servicio público que brindan y porque saben que son

para el ejercicio de los derechos sociales y de los derechos fundamentales también a personas como luna la voluntaria de cruz roja cuya foto

le ha puesto en una violencia en redes que nadie nadie nadie

agradecer a todas las redes de acogida que trabajan y sobre todo a las personas que están en la calle y que viven en condiciones infrahumanas

y no vamos a parar hasta que todos los derechos sean reconocidos para todas las personas eskerrik asko

a la representante a la señora sánchez del pse quiero decirle que no manipule lo que ha dicho vox no ha dicho lo que usted ha dicho nada que ver usted ha dicho que queremos paralizar las ayudas a los trabajadores afectados por el covid diecinueve si lee bien la enmienda en el punto dos precisamente hemos dicho todo lo contrario

entendemos que malinterprete esto porque efectivamente ustedes no son mucho de ayudar a los trabajadores lo estamos viendo ahora con la subida que quieren hacer

para ustedes todo es subir los impuestos entonces todo que no sea esto desde luego la ayuda a los trabajadores no la veo por ningún lado a la señora gonzález solamente le voy a decir una cosa nosotros no vamos a entrar en este debate demagógico que ustedes traen porque

el líder de esta izquierda del presente bien podría ser el papa de roma el papa francisco porque está claro que su política no es de este mundo muchas gracias

no se trata de ayudar a la gente se trata de generar condiciones

y de asumir las responsabilidades públicas que a cada cual le corresponde se trata de eso no de generar de ayudar

se ha hecho esto en colaboración con el tercer sector

de protección no tenía capacidad para responder a este tipo de situaciones y se ha buscado esa colaboración que por otro lado una pregunta que le hacía a la consejera ya me pareció un poquito así que después de la respuesta que dieron se tardará tanto en pagarles porque en la última liquidación que llegó del fondo covid pues no se habían hecho efectivos los pagos correspondientes a estos

que se ha atendido a todas las personas no se puede afirmar eso porque si usted habla con esas entidades que se nos sugería hablar pues queda en evidencia la insuficiencia de plazas la necesidad de nuevos recursos de nuevas respuestas

bada pues que el gobierno siga haciendo lo que tiene que hacer con la colaboración del tercer sector eta hori

gonzález he señalado en mi primera intervención que se han hecho diferentes actuaciones

esa experiencia que se ha recogido y que se ha tenido y se ha llevado a cabo durante todo el periodo de duración de la pandemia hasta ahora desde el inicio son medidas que se van a tener en cuenta y toda esta experiencia se va a tener en cuenta

sin hogar que se va a realizar de nuevo usted señalaba que lo que querían era una comisión de coordinación pero es que lo que

le he señalado es que esa coordinación se está llevando a cabo a través de la comisión que está ahora mismo creada con lo cual es que ya está creada que es lo que yo le defendía en mi primera intervención y señora

gonzález está llena de odio y de racismo y de un patriotismo mal entendido con el que no estamos en absoluto de acuerdo

ha defendido y defenderá los derechos de los trabajadores cosa que ustedes no hacen nosotros

que vamos a apoyar la enmienda transaccional que hemos acordado entre el grupo nacionalista vasco el grupo socialista y el grupo popular ciudadanos

creada porque ya está creada junto al resto de instituciones y al tercer sector social a raíz de la covid diecinueve para evaluar los programas y puesta en marcha

sin hogar teniendo muy presente toda la situación de la pandemia y por otro lado a que evalúe la estrategia vasca para personas

y que elabore una nueva estrategia que se centre en los nuevos perfiles que han surgido de la pandemia y en las conclusiones de dicha valoración y esta es desde luego la propuesta que nosotros vamos a apoyar nada más

konformista horretatik ez da que el gobierno haga lo que tiene que hacer o que siga haciendo lo que tiene que hacer ez da que el gobierno siga haciendo lo que ya estaba haciendo y que mejore lo que tenga que mejorar y que siga velando por los derechos de las personas sin hogar hori da gure

señora gonzález ha dicho usted

en la estrategia de vacunación bueno quiero que sepa que el gobierno ha participado en conversaciones con el tercer sector social y que se está llegando a acuerdos para que las personas

tengan un trato específico en la campaña de vacunación y le comento por si no lo sabía que muchas de ellas seguramente van a recibir la dosis de janssen

que sufren estas personas puede ser más adecuada por la identificación o por poder acceder a ellas a la hora de vacunar luego hoy no se lo he oído pero otras muchas veces

lo triste que está porque no ha sido capaz de llegar a un acuerdo lo importante que es llegar a un acuerdo

pero quiero que sepa que para llegar a un acuerdo hacen falta varias cosas lo primero de ello la primera de ellas es hablar

con ese buen tono que le caracteriza y por esa parte nosotros se lo tenemos que reconocer otro aspecto que es importante a la hora de llegar a un acuerdo es mostrar voluntad dudamos un poco porque el texto que usted nos remitió como propuesta

planteábamos nosotros y finalmente creemos que es importante también

escuchar y con respecto a escuchar creo que le tengo que recordar que esto es una moción consecuencia de interpelación de una interpelación que usted

planteó el escenario tal y como usted lo veía recibió una respuesta por parte de la sailburu que iba en la línea de lo que yo he comentado hoy o mejor dicho lo que yo he comentado hoy iba en la línea de lo que le respondió la sailburu y después en su segundo turno usted

a las personas en situación de sinhogarismo de hacer políticas

del neoliberalismo de aplicar políticas capitalistas que seguramente a ella

también le acusó de aporofobia y también le acusó de necropolítica eso sí

que no le iba a acusar de matar a nadie directamente sino de aplicar políticas que poco a poco iban matando a la gente

usted salió con eso demostró que mucho no escuchó y en este sentido para terminar sí que me gustaría agradecer a la señora garrido y a la señora sánchez la disponibilidad que han mostrado para poder alcanzar

buenos días señorías traemos hoy a esta cámara

el desarrollo y la innovación en euskadi es una propuesta que tiene dos objetivos fundamentales uno que se incremente la inversión

con el fin de lograr lo antes posible la convergencia con europa

dar una oportunidad laboral y profesional a todos esos investigadores que en euskadi se encuentran haciendo una labor tan importante de una forma a veces tan precaria encadenando contratos temporales de corta duración porque las ayudas a su contratación no duran más de cuatro años o en el peor de los casos tienen que irse al extranjero en busca de una oportunidad lo que supone una pérdida

y una pérdida de talento que no nos deberíamos poder permitir siempre he tenido la impresión

no les otorgamos el papel social que les corresponde y que no les damos la importancia que se merecen quizás es porque no somos conscientes de hasta qué punto su trabajo impacta en nuestra vida diaria o en nuestra economía nos pasa con muchas cosas que no tienen un retorno inmediato

entre la actividad que se realiza y el resultado que se obtiene y en este caso es evidente porque la investigación tanto la básica como la aplicada es un trabajo

y para la que se necesita una visión a largo plazo y una constancia que no son muy frecuentes en nuestra sociedad actual en la empresa privada por un lado se demandan resultados económicos

y en la administración pública por otro estamos condicionados por los ciclos políticos de cuatro años sin embargo la investigación requiere ciclos más largos

para poder obtener resultados pero por encima de todo eso

y es que sin investigación no hay progreso económico ni social

hemos debatido aquí asuntos íntimamente relacionados con la investigación o mejor dicho problemas graves causados por la insuficiente investigación como por ejemplo la crisis del sector aeronáutico o la crisis del sector automovilístico y hoy mismo

otro asunto que depende directamente de la investigación el tema de las baterías para automóviles

en la que la única salida ha sido como siempre la investigación y es que la investigación nos salva sin investigación en este caso es evidente no tendríamos vacunas

seguimos sin prestarle la atención debida a la investigación y sin reconocer a los investigadores su enorme aporte a la humanidad no sé por ejemplo cuántos de nosotros decir

los nombres de los principales investigadores que han descubierto la vacuna o han colaborado en ella contra el covid pero es evidente que han quedado en un segundo plano de la actualidad y de la prensa

no tienen el reconocimiento social que merecen desde aquí deberíamos aprovechar para lanzarles un saludo

por todo el esfuerzo que han realizado y por el esfuerzo que realizan en esa labor sorda callada oculta a veces de ratones de biblioteca o de ratones de laboratorio que hacen

pueda progresar y a quién le corresponde socialmente la responsabilidad de la investigación porque ya sabemos que los partidarios de que todo sea público cuando llegan los datos que muestran los déficit de investigación de un país miran hacia el sector privado y que a su vez este reclame

y es que es evidente que este es uno de los temas en los que la colaboración público privada no es solo necesaria sino indispensable como tantos otros como la sanidad la educación

en este caso es evidente es imprescindible esa colaboración para avanzar en la dirección correcta y en esa dirección va también nuestra propuesta pero actualmente cómo en la situación de la

informe el plan de ciencia y tecnología dos mil treinta en el que en su presentación en su primera página el lehendakari dice nuestra visión

nuestro objetivo dice es mejorar el nivel de vida y la calidad del empleo esta es una estrategia compartida en la que participamos las instituciones públicas las empresas las universidades los centros de investigación los centros tecnológicos y los agentes socioeconómicos pero en dos mil doce euskadi destinaba el dos coma nueve por ciento

y este valor ha ido descendiendo hasta llegar al uno coma ochenta y seis por ciento

se invirtió en dos mil diecinueve quinientos millónes de euros redondeando que representan

y eso significa el cero coma sesenta y dos por ciento del pib si la administración pública vasca

de desarrollo económico incrementase la inversión al ritmo del seis por ciento anual no convergeríamos con europa antes del dos mil cuarenta por tanto si bien celebramos los compromisos anunciados por la consejera tenemos que decir que no es suficiente para llegar a una convergencia real en un tiempo razonable por tanto

en los últimos años en dos mil diecisiete euskadi era por ejemplo la región ciento diecisiete

en innovación en europa en dos mil diecinueve dos años más tarde

la tendencia que está mostrando euskadi con la innovación europea es negativa

por tanto si bien muchas de las estrategias y ayudas desplegadas por el gobierno vasco

en global creemos que falta está demostrado que falta impulso innovador es verdad que en euskadi se invierte más

que hace nueve años que es cuando el lehendakari urkullu por ejemplo llegó a ajuria enea

y también es verdad que el resto de las regiones europeas están invirtiendo mucho más rápido y mucho más que nosotros esta es la razón por la que entre dos mil diecisiete y dos mil diecinueve nos hayan adelantado quince regiones en el indicador de la unión analizando por componentes estos datos

son las empresas mientras que la administración invirtió

más las empresas aportan

de euskadi y sin ellas pasaríamos de ser una región de innovación clasificada como moderada a una región de innovación modesta gracias a las empresas privadas

aquí presentes denostan somos referentes en algunos sectores industriales por otra parte nos encontramos con un grave problema de temporalidad de los investigadores

personales y profesionales es muy complicado desarrollar un proyecto de vida un proyecto de familia cuando uno no sabe cuánto le va a durar su contrato cuando su contrato tiene un periodo de caducidad muy corto y cuando además

decía severo ochoa que la investigación necesita más cabezas que medios pero en este caso todos sabemos que ahora ambas cosas tienen que ir unidas porque a las cabezas hay que pagarlas adecuadamente para realizar tarea investigadora

consistente en un incentivo para empresas a la contratación de nuevo personal investigador otorgado en un periodo de cuatro años compatible con el resto de ayudas existentes y desarrollado con la siguiente fórmula un primer año se subvencionaría el equivalente al cien por ciento de las aportaciones empresariales a la seguridad social

en el segundo año se subvencionaría el setenta y cinco en el tercero el cincuenta y en el cuarto el veinticinco esta medida

por una parte fomentar la iniciación de nuevos proyectos innovadores en empresas vascas asegurando y facilitando la contratación de personal para llevarlos a cabo en segundo lugar incrementar el número de investigadores en empresas un cinco por ciento estaría bien como objetivo

y en tercer lugar prolongar la ayuda durante al menos cuatro años con el fin de dar una cierta estabilidad profesional a los investigadores

ya que las ayudas se prolongan durante cuatro ejercicios desde su contratación por todo ello hemos llegado a un acuerdo con los grupos que apoyan al gobierno y desde aquí les quiero agradecer su voluntad negociadora que creo que es el camino en el que tenemos que trabajar en esa transacción proponemos que se continúe

más primero con el objetivo de que euskadi se mantenga entre las regiones europeas con alta innovación

y continuar ofreciendo programas como por ejemplo este que aquí proponemos u otra fórmulas de apoyo a la formación incorporación en el tejido empresarial de personal investigador para la consecución de este objetivo y en tercer lugar promover la igualdad de género

la igualdad de oportunidades de derechos y obligaciones tengamos en cuenta que la convergencia con europa tenemos que trabajarla porque de momento como decíamos cada vez estamos más lejos de ella esta es la razón por la que es necesario que sigamos implementando medidas eficaces

que ha presentado bildu consideramos que la primera propuesta de alcanzar el tres por ciento es interesante

pero nos falta concreción respecto a cómo hacerlo en la segunda parte

que a nosotros nos parece que no es que sea mucho ni poco nos parece poco pero es que no nos parece que tenga ningún sentido

e instituciones privadas sin fines de lucro en segundo lugar porque definir un salario mínimo diferente para cada grupo profesional no tiene sentido nos parece que va en contra

de justamente de la filosofía precisamente se trata de un mínimo y por tanto el mínimo debería ser más o menos común

y es verdad que ya el gobierno vasco tiene otras ayudas dirigidas a facilitar la contratación de investigadores por parte

no están siendo suficientes para conseguir el objetivo y nuestra propuesta es aportar más ideas es aportar ayudas complementarias a las ayudas existentes

pero debe quedar claro que esta iniciativa busca ser una iniciativa de consenso dentro de un marco general que pretende posicionarnos como referentes

que europa no se vaya alejando de nosotros y si fuera posible y fuéramos capaces de invertir más

como ustedes saben nuestro grupo parlamentario es un firme defensor de la importancia que tiene la inversión en innovación

porque consideramos que la innovación sienta las bases del desarrollo futuro de las regiones

y genera empleos de calidad pero somos conscientes de que esta iniciativa por sí sola

pero sí que creemos que va en la buena dirección y que hay que ir trabajando y hay que seguir aportando ideas al respecto

que seguiremos trayendo más iniciativas de este tipo en este sentido unas serán más importantes y otras más modestas pero todas tendrán el objetivo de en la convergencia del gasto con la unión europea y este es un concepto que quiero resaltar el de la colaboración porque la iniciativa que hoy aprobaremos es una iniciativa constructiva concreta y creemos que relativamente fácil de implementar vuelvo a mostrar mi compromiso en colaborar aportar y mejorar en todas las iniciativas que traigan el resto de los grupos parlamentarios

el problema es que seguramente hablamos poco de un tema tan relevante para los ciudadanos como es el de la investigación en el que creo que compartimos todos el fin pero

presidente andrea señor gil ha

y la brecha existente con los países de nuestro entorno y la unión europea que no le voy a rebatir

partiendo del hecho de que el conocimiento y la innovación son esenciales para mantener y mejorar el bienestar social y el crecimiento económico algo que me alegra que coincidamos en esta cámara la inversión española en conocimiento ha alcanzado en dos mil diecinueve su máximo histórico

y registrando su quinta tasa de crecimiento consecutiva a esta evolución positiva han contribuido tanto el sector público como el privado

ha registrado también su máximo histórico tanto en términos de inversión como de empleo

sin embargo el sector público aún no ha logrado superar los niveles previos a la crisis económica ni en inversión

lejos de los niveles precrisis y de los objetivos del dos por ciento que establecía el plan estatal de investigación científica técnica e innovación

euskadi por su parte se sitúa en el uno coma noventa y siete por ciento lo que le sitúa en la comunidad autónoma con mayor gasto en investigación y desarrollo en relación con su pib del estado

millónes de euros si bien es cierto esta trayectoria contrasta con europa que ya invierte un treinta y uno por ciento más que antes de la crisis

ya que si tomamos la media europea como índice cien la renta per cápita en nuestro país es noventa y uno mientras que la inversión

con esta información adicional lo que quiero exponer son dos ideas primero

en investigación y conocimientos previos a la crisis y en segundo lugar que tiene potencial económico y margen de inversión para estrechar la brecha con europa

con un incremento del cincuenta y nueve coma cuatro por ciento de la inversión directa

la reconstrucción social y económica que se aprobó en el congreso el pasado mes de julio y donde los fondos europeos para la recuperación económica van a representar una oportunidad para avanzar hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada y para afianzar estos objetivos se ha lanzado el pacto por la ciencia y la innovación que incluye tres compromisos de mínimos en financiación pública

estabilidad para las agencias y promoción del talento un pacto que plantea que la financiación pública del sistema de ciencia e innovación

y el uno coma veinticinco en dos mil treinta lo que sumado a la aportación del sector privado

en dos mil treinta como recientemente ha propuesto la unión europea además el pacto

equivalente a la de los países más avanzados y que cuente con los medios materiales y administrativos adecuados desde que empiezan a trabajar y precisamente el primer paso para mejorar la carrera científica es a través de la reforma de la ley de ciencia los objetivos de esta reforma es crear una carrera investigadora atractiva y estable e

por tanto como digo el primer objetivo de la reforma es conseguir que los investigadores tengan una carrera atractiva predecible y estable que permita atraer y retener el talento el gobierno propone la creación de un modelo de contratación utilizado en estados unidos canadá y ocho países europeos

con este modelo la entrada al sistema garantizará la igualdad de oportunidades y que se premie el talento y la dedicación real

con más y mejores contratos en la fase postdoctoral inicial y con ayudas a los contratados para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos por su parte en euskadi contamos con el plan estratégico de ciencia tecnología e innovación que prevé la inversión de doscientos dieciocho mil seiscientos millónes hasta dos mil treinta

se trata de un plan que consolida la apuesta estratégica de euskadi para la investigación e innovación centra buena parte del mismo a través de sus pilares estratégicos y sus objetivos más operativos promover y gestionar el talento científico tecnológico y empresarial

entre ellos destaca por ejemplo el programa ikerbasque o el talentua ikaskuntza por parte de las diputaciones por tanto son muchas las ayudas que se plantean tanto a nivel nacional como de nuestra comunidad autónoma en torno a la contratación de personal investigador

a conseguir que tengan una carrera atractiva y estable y a trabajar en un sistema para atraer talento temprano acorde a los países más avanzados nunca antes había sido tan evidente la necesidad de una política de estado para la ciencia y la innovación una política merecedora de máximo consenso porque va a ser esencial para acelerar la recuperación y más allá garantizar la prosperidad a largo plazo

español de ciencia tecnología e innovación con nuevos programas complementarios del gobierno con las comunidades autónomas

en nuestra opinión es primordial contar con una buena gobernanza alinear y coordinar bien todos estos programas de ayudas y apoyo y contemplarlos desde una visión más global e integradora

ya que de esta forma hemos enriquecido la misma y contemplamos más programas y fórmulas de apoyo

valoramos positivamente para terminar me gustaría hacer una reflexión sobre los factores que determinan la atracción y retención del talento ya que son de muy variada naturaleza el progreso de una sociedad moderna depende cada día más del talento del que dispone por ello se han realizado recientemente esfuerzos para medir su nivel y su evolución

global de competitividad en atracción y retención de talento publicado desde hace cinco años donde españa se sitúa en la oposición treinta y uno de ciento diecinueve países este índice está compuesto por seis grandes pilares que describen la facilidad para generar atraer retener talento

y de instituciones de excelencia generadoras de conocimiento las comunidades que ostentan las primeras posiciones del ranking global son las comunidades de madrid

el país vasco lidera el pilar de facilitar el talento que analiza las condiciones del entorno y destaca de manera muy notable las capacidades técnicas y las de conocimiento lo que sitúa a euskadi en mejor posición para seguir trabajando en estrechar la brecha con europa

es la necesaria lucha a favor de la igualdad en la ciencia somos muy conscientes de las brechas de género que persisten en nuestro sistema de ciencia tecnología e innovación principalmente para atraer

y hay que trabajar para erradicar estas desigualdades y aprovechar al cien por ciento el talento de la mitad de la población especialmente en el ámbito privado donde el mayor peso del empleo

respecto al sector público que se sitúa en un cincuenta y uno por ciento eso tendrá un efecto muy beneficioso para todo nuestro sistema de ciencia e innovación

y en el primer punto de nuestra de la transaccional firmada con el grupo pp ciudadanos pedimos que se continúe

es cierto como señalaba en su iniciativa el grupo pp ciudadanos que no hemos logrado la convergencia con europa que en relación al pib estamos aún por debajo de la media europea pero ese dato necesita acompañarse de otros que el grupo

nuestro gasto año a año ha ido creciendo y lo lleva haciendo tal y como recogen los informes de eustat cinco años seguidos este año vamos a alcanzar quinientos treinta y cinco millónes

aunque nos queda camino por recorrer tenemos el compromiso un compromiso el compromiso del gobierno vasco de aumentar un seis por ciento su presupuesto anual de apoyo a la investigación el desarrollo y la innovación un compromiso y un hecho objetivable aunque no alcanzamos la media europea lideramos continuamos liderando el ranking del estado

en la que más se cuida a este sector pero consideramos que hay que seguir trabajando y mejorando y por ello solicitamos al gobierno que haga el esfuerzo e inversión necesaria para

para poder mantenernos entre los países europeos con mayor innovación y no solo instamos al gobierno sino que solicitamos este esfuerzo

público privados ya que como he mencionado al inicio es importante poner recursos sí pero también es importante la planificación las sinergias y la colaboración público privada

que ya lo ha explicado el señor gil para favorecer la contratación de investigadores esta propuesta incide en la dimensión de recursos humanos que por cierto

esta dimensión euskadi obtiene buenos resultados es más

dos mil veinte nuestra comunidad obtiene mejor puntuación que la media europea en las tres dimensiones que la componen recursos humanos sistemas de investigación atractivos

egun on guztioi hablamos de una cuestión muy relevante y en este sentido

haya dado la oportunidad a los grupos parlamentarios de poder debatir respecto a esta cuestión que seguro que

para empezar en las próximas semanas la comisionada nos vendrá a explicar

mucho mayor tiempo la capacidad de abordar los objetivos del gobierno vasco en relación con esta cuestión en cualquier caso por empezar por la coyuntura actual decir que el impacto de la crisis social y económica del covid ha demostrado lo que prácticamente casi todos los grupos parlamentarios que han intervenido y ahora mismo el mío propio

la importancia de la ciencia no solo está vinculada con la capacidad de innovación y de mejoras tecnológicas de cara a la

sino que también es un elemento fundamental para prever y adelantarnos a circunstancias como por ejemplo la emergencia sanitaria derivada del covid y también para dar soluciones

resulta también un poco irónico diría yo que prácticamente todos los grupos parlamentarios que aquí salimos a hablar mencionamos la relevancia de la ciencia y de su desarrollo y del gasto público ligado a su promoción que a su vez asumamos como ha hecho la señora pérez que la práctica de los recortes de las últimas décadas o de la última década mejor dicho

no estemos en las cifras de gasto y de inversión que

antes de las crisis económicas que se han derivado en los últimos años para nosotros y para nosotras resulta irónico porque si fuese así la apuesta se habría reflejado con denodado interés por parte

el recuperar esos grados de inversión por otro lado respecto a la cuestión segunda que se refiere al planteamiento a la medida que plantea su grupo y que ha sido asumida por parte de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno

nos parece bien porque quién iba a estar en contra de que tengan mejores condiciones laborales o económicas los investigadores e investigadoras pero sí decirle también que desde luego

que esto como se ha dicho tiene que ver con un elemento estructural que es la precariedad que ha venido parece ser para quedarse si es por parte de su grupo y que si acaso se puede combatir en este caso sí con subvenciones públicas resulta también irónico que lo que en ocasiones son subvenciones

en otras ocasiones las subvenciones para otros aspectos sean gasto es decir que cuando la administración pública utiliza dinero público para subvencionar costes salariales de empresas privadas sin aportar ningún tipo de condicionante porque usted en su propuesta

a ningún condicionante respecto a la percepción de este cheque de

pues en esos casos sí parece que ese gasto público está ligado a la posibilidad de aumentar la capacidad inversora y productora de las empresas públicas pero sí

al mantenimiento del estado de bienestar en ese sentido ya lo consideran gasto o desde luego no lo consideran oportuno

no nos parece a priori mal pero desde luego no nos parece como ya le decía la solución al problema de la precariedad de los investigadores e investigadoras

en ese sentido lo que se tiene que hacer es desde las administraciones públicas fundamentalmente tener un compromiso claro por el cumplimiento de lo que tiene que ver con las

el aumento de las becas de investigación y también con apalancar más gasto público por parte de las administraciones públicas de cara a establecer compras de carácter innovador y a su vez también a poner en marcha cada vez más proyectos conjuntos

ligados al plan de ciencia tecnología e innovación y que estos se cumplan es decir que no pase como con el actual plan que mucho de lo que figura en el mismo como objetivos no se han llevado

de género o a la falta de mujeres en la actividad investigadora

resulta preocupante es una realidad que viene dándose desde hace prácticamente desde los inicios del proceso de

del desarrollo científico y tecnológico la falta de mujeres en este campo y es verdad que sí que hay

plantear soluciones a esta cuestión y en este sentido pues generales respecto al punto que también es valga la redundancia bastante general

vamos a votar favorablemente a la iniciativa transaccional pero ya le digo diciéndole que respecto al primero creemos que el objetivo de

euskadi entre las regiones europeas con alta innovación es decir llegar

pues nos parece insuficiente cuando ya la unión europea afirma que tenemos que llegar al tres por ciento y bueno en ese sentido creemos que usted estará de acuerdo luego con respecto a la segunda al segundo planteamiento ya se lo he explicado creemos que no es la panacea no afronta la realidad de la precariedad que es un problema a día de hoy estructural no solo en el campo de la investigación y la ciencia sino en muchos más y respecto a la promoción de la igualdad de género en el ámbito del personal investigador pues qué decirle es difícil no sumarse a ello

con más profusión y con planteamientos más concretos pero en cualquier caso como usted decía en su primera intervención procuraremos siempre sumarnos

que vayan en la línea de mejorar y promover las condiciones laborales o

y más ahora con los fondos europeos y con el debate que hay respecto a la cuestión de la reformulación del tejido productivo de nuestro país que es una cuestión prioritaria y en este sentido decirle que lo apoyaremos pero que creemos que

apartados y que no atiende a otros que no se han incluido en la transacción

todos parece que todos algunas cuestiones como por ejemplo el apoyo

en este parlamento y lo que nos hacía falta sin duda es traducir esto en cuestiones concretas para llevarlo adelante

en investigación pues hagámoslo porque podemos hacerlo y es necesario

yo no creo que en este tema haya que se triunfalistas es decir creo que no podemos ser triunfalistas de ninguna manera

que como siempre los números y las comparativas se puedan hacer en un sentido o en otro y siempre encontramos gente que lo hace peor que nosotros y otros que lo hacen mejor pero es igual la cuestión es muy sencilla

y necesitamos invertir bastante más en los investigadores y en la investigación porque es un tema en el que repito nos va la vida nos va la vida futura no sé si ustedes saben cuánto cuesta hacer una tesis doctoral

no no me refiero solo en dinero me refiero en tiempo y esfuerzo algunos sí que lo sabrán porque a lo mejor han pasado por ahí no pero a mí me ha tocado en la vida dirigir muchas tesis doctorales y sufrir

que las hace todo el proceso el larguísimo proceso que supone una tesis doctoral y saben ustedes para qué sirve bueno realmente es la puerta de entrada a la investigación es decir

que uno no está capacitado para hacer investigación la investigación se hace justo para capacitarse para esto no pero saben ustedes para qué sirve socialmente económicamente saben ustedes cuánto cobra un doctor

de cuál es la media pero lo que sí que tengo es la sensación clarísima de que estas dos cosas están en clarísima desproporción es

está muy desproporcionado y así nos pasa lógicamente que la gente se lo piensa mucho antes de iniciar una carrera de investigación porque no merece la pena así de sencillo

es decir no está compensado y además es que la investigación hoy solamente se puede hacer con ayudas públicas es muy complicado hacer investigación sin ayudas públicas

y creo que esto no hay que hacerlo señor soto con subvenciones

es decir usted sabe que el trabajo es el elemento económico más castigado fiscalmente es decir el que más costes tiene y lo que estamos diciendo es que

pero no subvenciones porque si no efectivamente estaríamos topando una vez más el sistema y estaríamos haciendo

para reactivar el sistema para cambiar las cosas estructuralmente no para generar dependencia y claro que estoy de acuerdo en que la

no es suficiente pero ahora mismo estamos lejos con lo cual la primera meta para ser realistas

ojalá pudiéramos plantearnos ser los campeones del mundo en esto pero seamos realistas hoy por hoy todavía fíjense que estamos hablando del seis por ciento de incrementos anuales y ya hemos dicho que con el seis por ciento de incrementos anuales no llegamos a la convergencia con europa

luego creo que esto hay que modificarlo y cambiarlo hay que invertir más y si conseguimos esto ya hablaremos de de más cosas pero señor soto yo no le he oído

no he oído sus propuestas y creo que este tema merece la pena que todos

es modesta es humilde es una claro que no es la panacea

busquemos la forma de hacer avanzar la investigación y de apoyar a los investigadores en euskadi no solamente

por los beneficios económicos que tienen sino también por los beneficios sociales que tendría para todos porque eso repercute

administraciones vascas están involucradas al cien por ciento para lo público es una prioridad mejorar tejido productivo hacerlo más inteligente más verde más innovador

lo que quiero trasladarles es que reconociendo que no alcanzamos los estándares europeos

por la buena dirección y que hay un esfuerzo importante por parte de las administraciones vascas gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos para situarnos entre las regiones europeas con alta innovación

así lo refleja eustat en la nota publicada el veintiocho de octubre del dos mil veinte que decía el panel europeo de indicadores de innovación europea

con datos referidos al dos mil nueve prácticamente idéntico al de la media de la unión europea de los veintisiete con un valor de cero coma quinientos siete

al obtener una media superior al noventa y cinco por ciento de la registrada por la unión europea de los veintisiete este debe ser nuestro objetivo como país

debemos de mantener y arrogarnos como un país con alta innovación eta azken minutua zuzendu nahiko nioke egunez egun ikertzaileen lana aldarrikatzen

constructores europeos constataba que esto es una realidad ya y del millón y pico o

sea de total de vehículos vendidos en europa en el primer trimestre de este año un millón tienen algún tipo de electrificación

vehículos eléctricos puros como una subida del cincuenta y cinco por ciento en ventas

así que la tendencia entendemos que es imparable los nichos de oportunidad están ahí pero también es verdad que hay amenazas asociadas

de europa deja poco lugar a duda el cambio de motorización hacia el vehículo eléctrico puede suponer una reducción en alemania del veinticinco por ciento de los vehículos de los vehículos no empleos industriales asociados a la fabricación de los vehículos

daba números muy similares para toda europa y la razón es muy sencilla y es muy conocida

sobre todo porque el sistema de propulsión es mucho más simple

los cambios en la modalidad de transporte el vehículo compartido la movilidad como servicio la automatización de los procesos de fabricación avanzada etcétera así que la pregunta no es si se pueden mantener los empleos actuales sino

el balance de empleo puede ser positivo por lo menos no negativo y resolver esta duda para nuestro país que es completamente crucial

porque hay mucho y se hace en términos generales bien pero

y entendemos que a medio plazo la respuesta es evidente hay que entrar de lleno en la transformación es más habría que

impulsarla esta moción en cualquier caso o esta propuesta y la

no pretende llegar a tanto y ni siquiera hoy pretendemos resolver muchas de las cuestiones relacionados con la electrificación del parque móvil

decía que había que mejorar en todo este pack de transformación digamos no hoy nos hemos

en unos de los aspectos clave en el proceso de electrificación sobre todo de vehículos ligeros pero que está estrechamente ligada

del sector de la automoción es decir la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos y por dos motivos principales el principal o uno de ellos es que las baterías en los vehículos eléctricos es el alma

y dentro de la batería se podía decir que la fabricación de celdas es el elemento

sobre el cual entendemos que estamos bastante bien situados y en números gruesos decíamos que la batería supone casi la mitad del peso del precio del valor incluso el beneficio de un vehículo eléctrico así que quien no haga baterías en el futuro lo va a tener muy complicado en el sector

y el otro motivo también importante es que la batalla por la fabricación de las baterías de vehículos eléctricos se está jugando hoy tanto a nivel mundial como a nivel

se están sucediendo constantemente hay muchos proyectos pero resulta que pueden no llegar a ser suficientes si atendemos al reciente estudio del grupo suizo abb nos decía que la capacidad de producción de baterías debe aumentar considerablemente para poder hacer frente a la demanda proyectada en los próximos años a día de hoy europa

que es el trece por ciento de la demanda mundial y la aspiración es según la estrategia de la unión europea que para dos mil veintiocho

un veinticinco por ciento esto obligaría a tener instalado una capacidad de producción de trescientos gigavatios en batería de cuatrocientos perdón y

a día de hoy con lo que está proyectado para que se pueda construir en capacidad de construcción de producción de baterías estaría en unos trescientos gigavatios así que si se cumpliera o

eléctrico puede ni siquiera va a estar con todo lo que se está proyectando podía haber un cuello de botella productivo así que entendemos que el nicho es evidente y las

egun on voy a empezar

que ha presentado nuestro grupo en relación con la necesidad de un plan estratégico referido al sector del automóvil en euskadi y en este sentido

voy a comentar algo que el señor otero ya ha planteado y es que la dependencia extrema de euskadi

no puede ser en nuestra opinión sustituida por una nueva dependencia del sector del vehículo privado partimos de esa base creemos que no se puede poner todos los huevos en la misma cesta y creemos que es necesario diversificar y en ese sentido

estratégico el sector del automóvil sufre una sobrecapacidad de producción y una demanda a la baja en dos mil veinte se vendieron en españa

podría concluir que esto tiene algo de relación con la pandemia pero es que el sector también se vio afectado en dos mil diecinueve con una bajada en las ventas de un cuatro coma ocho por ciento

abogan por una reducción en el uso del vehículo privado y apuestan fuerte hacia el cambio modal del vehículo privado al transporte de masas público como son el tren metro tranvía o autobús creemos que aquí euskadi tiene que hacer una reflexión

quiere ligar la inversión en baterías eléctricas si

de masas cuando no se vendan coches eléctricos

a derrochar dinero público en planes renove para aumentar la demanda de un modelo de movilidad que es insostenible

con gran parte de la población mundial sin capacidad de adquirir un vehículo privado tenemos cuellos de botella de semiconductores peleas geoestratégicas por el litio y acumulación de residuos en forma de baterías

e impulsar nuevos nichos de mercado es el caso de la investigación y fabricación de baterías pero no para el vehículo privado sino como decía para el transporte de masas

para que instale una fábrica de autobuses eléctricos en euskadi en vez de en polonia

aviones trenes o autobuses sin emisiones de ce o dos no tenemos que apostarlo todo una vez más al sector del automóvil privado aunque sea eléctrico

y tener claro que este planeta no tiene capacidad de recursos para sustituir todos los vehículos

por eléctricos tampoco tenemos muy claro el ámbito de la inversión en proyectos de baterías eléctricas en euskadi como decía y es que otro nicho de mercado de las baterías es su uso como almacenamiento energético y como fuente de respaldo para las interrupciones de suministro que tienen en energías renovables como la solar o la eólica incluso baterías para favorecer el autoconsumo energético

y en euskadi apenas hay proyectos en este ámbito y por comentar otro nicho de mercado para diversificar el tejido industrial vasco en torno a las baterías y la movilidad

la dependencia actual al litio o cobalto del exterior descubrir el uso materias primas la reutilización y reciclaje de las baterías incluso como hemos comentado al inicio también ir hacia otros modelos luego lo comentaré referido al plan concreto que se tiene respecto a la gigaestructura que se quiere hacer de baterías eléctricas en álava pero básicamente que es necesario un plan de diversificación y no solo ligarlo a la producción de baterías eléctricas para automóviles privados creemos en relación con la cuestión concreta del proyecto que este se propone ligado a que

establezca lo que tiene que ver con el ecodiseño del reciclaje se realice en euskadi que también decía que

que en euskadi han tenido un objetivo tractor innovador que no han resultado en un éxito sino más bien en un

hacer un plan de viabilidad que sería el primero de los puntos al que me refería pero yendo concretamente a la cuestión que se refiere

respecto a la posibilidad por ejemplo que se comentaba de colaboración y participación de mercedes u otras

territorio porque de hecho mercedes ya dispone de siete proveedores de baterías eléctricas entre ellas una empresa alemana llamada farasis y creemos que políticamente

a las alemanas en este sentido aunque habrá que hacer esfuerzos en ello por otro lado también es una operación la que tiene que ver con la que aborda toda la cadena de valor que es lo que pretendía decir antes pero en realidad la iniciativa tiene una entidad mucho mayor que está ligada a que es una iniciativa mucho más amplia

además de la vasca y que en ese sentido esto incluso también está todavía por determinar y cuál sería su implicación si se desarrolla finalmente y si esto tendría cabida en euskadi creemos y lo vuelvo a decir por la incidencia en el empleo y en lo que tiene que ver con la política medioambiental que ligar como objetivo tractor en euskadi la convergencia

una opción de palanca económica pero desde luego no debiese ser la única ni desde luego debiese ser la fundamental creemos que hay que

hacia otros nichos de mercado que ya se están abordando en otros países como he mencionado en la primera parte de mi intervención para poder diversificar y efectivamente ligar las pérdidas de empleo a sectores como los que comentaba para que no se pierdan los empleos que el señor otero mencionaba como riesgo de posibilidad real

en sí mismo que se quiere plantear decir que a día de hoy como decía existen aun serias dudas o en fin no de su bondad

en el territorio sino a que existen aun serias dudas respecto a si tendríamos la capacidad de ligar esta inversión con empresas privadas

conocimiento respecto a si mercedes u otras empresas de producción de automóviles estarían dispuestas a entrar en colaboración o comprar o aceptar

y en ese sentido a la falta de datos respecto a esto planteábamos

respecto a otros proyectos que en base a una burbuja de inversión también autorreferenciada en estudios

en lo que tiene que ver con el diseño y la promoción de un proyecto que luego no termina en nada provechoso y ahí hay ejemplos prácticos en los últimos años

respecto a ello nuestro grupo parlamentario en principio

de negociación respecto a la transacción en ese sentido agradecemos la voluntad del señor otero

todo a la cuestión de la gigafactoría y

tampoco nos parecía que fuese difícil porque creemos que habría acuerdo en relación con la necesidad de abordar

la voluntad de abordar más nichos aparte de este y luego por otro lado lo que entendemos que igual ha suscitado el no acuerdo tiene que ver con vincular la oportunidad de la ciudad factoría con un plan de viabilidad

debiese de ser ningún problema el hacerlo entonces en cualquier caso nos abstendremos porque tampoco tenemos intención de oponernos al proyecto básicamente como decía creemos que al que tiene que ir la movilidad en europa y en nuestro país en lo que se refiere a la construcción o elaboración de baterías eléctricas debe estar más

los coches o vehículos privados que creemos que progresivamente además van a ir a la baja eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

gracias señora presidenta la moción que hoy debatimos está ligada

la importancia y la preocupación por el sector automovilístico vasco la necesidad de anticipar los cambios radicales que se están produciendo en este sector

la conveniencia de situarse adecuadamente en el nuevo mercado del coche eléctrico y muy especialmente

de reconvertir a tiempo uno de los principales sectores productivos de euskadi asegurando el empleo futuro y a la vez manteniendo el empleo actual y lo que está en juego es muy importante en euskadi como todos sabemos en este sector tenemos más de trescientos empresas que facturan

empleos indirectos una barbaridad los cambios que se producirán

repercusión sobre toda la población a nivel económico y a nivel social

por la introducción del coche eléctrico como pueden ser los componentes metálicos de la carrocería o las propias ruedas

llevan años ya evolucionando y por cierto en euskadi ya tenemos empresas innovadoras y punteras en los sistemas por ejemplo de frenado o en los amortiguadores de adaptación inteligente

radical llevan años moviéndose y adaptándose a los cambios pero

de baterías para vehículos eléctricos primero veamos un poco el panorama mundial

de momento en esta carrera mundial el primer puesto con una cuota de más de sesenta y tres por ciento de la cuota de mercado seguido de lejos por europa con una cuota del quince por ciento y en tercer lugar está estados unidos

con una cuota del diez por ciento pero que ha decidido apostar muy fuertemente por este tema y ha anunciado

sector liderado como saben por tesla y sus socios

infinidad de startups muy bien dotadas financieramente

puede ser un buen ejemplo en europa como ya se ha dicho hay actualmente

unos quince proyectos en marcha buscando eliminar la dependencia de los fabricantes asiáticos hacia dos mil veinticinco produciendo celdas

entre los quince proyectos de fábricas de celdas de batería en europa se encuentran las que están en northvolt en suecia y alemania la del fabricante chino catl en alemania

la más grande del mundo según ha dicho elon musk su consejero delegado

para dos mil treinta de las cuales una podría estar en españa y podría ser en euskadi bueno para que esto sea posible

es la disponibilidad de la materia prima el litio y el cobalto son materiales muy escasos

y aquí pues no tenemos esto eso supone un

su transporte en el otro lado de la cadena de valor hacen falta clientes clientes

dispuestos a comprar y montar en su vehículo las baterías fabricadas es cierto que aquí podíamos mirar hacia mercedes pero no sé si

no tenemos tampoco muchas más posibilidades irizar en fin no hay muchas posibilidades

es la tecnología al menos a fecha de hoy simplificando la cuestión

actuales son de estado líquido es decir que estas tienen los días contados porque lo que va a sustituir es la tecnología de electrolito sólido

el problema de esta tecnología es que hoy todavía no está suficientemente madura como para pensar en una fábrica para ella como todos sabemos los coches tienen varios problemas actualmente los coches eléctricos su precio su autonomía la lentitud de su carga pero todos esos problemas tienen un común denominador las baterías

se han conseguido mejorar bastante tesla los ha conseguido mejorar bastante pero esta tecnología tiene importantes limitaciones que han hecho

y el electrolito sólido es un secreto a fecha de hoy entre los fabricantes

que en la investigación de john goodenough usan un electrolito de cristal

pero hay otros equipos trabajando con otro tipo de materiales como nanohilos de oro

por eso actualmente no tenemos ningún vehículo eléctrico que utilice baterías de estado sólido porque la tecnología todavía no está madura pero sin duda será la tecnología de almacenamiento de energía

la que nos va a producir prestaciones muy superiores

y en el tema de seguridad no es poco importantes recordemos el accidente que hubo

que se produjo justamente debido a este al problema de seguridad de las baterías

sin embargo esta tecnología aquí todavía no la tenemos disponible el profesor john kilner asesor del cic energigune nos dice

viables llevará unos pocos años más dice quizá de tres a cinco por tanto

son muy prometedoras pero hoy por hoy no es una tecnología madura

es el momento de incrementar los esfuerzos en investigación y de desarrollar un prototipo viable a continuación probar el prototipo que este funcione

si invertimos setecientos siete millónes de euros en la construcción de una gigafactoría de acuerdo con la información suministrada

corremos el riesgo de volver a cometer los errores que cometimos en el pasado con hiriko

se acuerdan es decir que quede claro este punto porque nuestra posición aquí es muy clara no nos oponemos

tendremos que hacerle un poco de caso y no empezar la casa por el tejado está claro y es aceptado de manera internacional que la tecnología actual de ion litio no es suficiente para las necesidades de los vehículos eléctricos

la batería de estado sólido además es una alternativa que parece que va ganando pero tampoco sabemos cómo va a acabar este tema

si es la tecnología que se impone en el futuro o puede salirnos mal si esa tecnología no es la que finalmente adoptan los fabricantes

porque fue protagonista de dos sonoros fracasos tecnológicos

y también de los videos de formato beta miles de millónes se invirtieron en una tecnología que si se hubiera adoptado hubieran posicionado a sony como líder del mercado pero no fue así

es importante por tanto innovar e invertir en baterías de estado sólido

y trabajar de su mano para asegurar que vamos por el buen camino mientras tanto aquí tenemos un proyecto que apuesta por la fábrica de baterías en estado sólido basquevolt planteado como un proyecto público privado porque no puede ser de otra forma en colaboración entre el eve y un buen grupo de empresas

y con una financiación de setecientos siete millónes de euros de los cuales doscientos diecisiete deberían venir de los fondos europeos pero es que según la información que sobre este tema remitió el gobierno a respuesta de una solicitud del grupo proponente observamos varios puntos preocupantes se solicitaron fondos para los años dos mil veintiuno dos mil veintidós dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro cuando los

en dos mil veintiuno se supone que se van a invertir quince millónes de euros en la gigafactoría y no tengo nada claro ni en qué ni dónde ni cómo en fin me temo que esa información a día de hoy sea de cero euros se pretenden obtener otros doscientos ochenta millónes de euros del innovation fund empezando en dos mil veintidós pero me temo que esto es otro brindis al sol

no porque no nos creyéramos esta sino porque sabemos que a veces cuando pedimos diferente información llega diferente respuesta y efectivamente es así

nos dijeron que se reducía la necesidad de fondos next de doscientos diecisiete millónes de euros a ocho

gracias presidenta consejera señorías buenos días pues

la ley de cambio climático española recientemente aprobada nos plantean un cambio

en un horizonte de veinte años en el que no se podrán vender vehículos que generen emisiones de ce o dos y a partir de dos mil cincuenta tampoco podrán circular los automóviles eléctricos e híbridos siguen siendo una minoría en euskadi y en europa

y nadie ya duda de que el futuro es suyo aunque en estos momentos ya haya un cuello de botella en europa porque faltan fábricas de baterías y lo hemos señalado

el gobierno de españa y el gobierno vasco un sector que además en el ámbito de la tecnología está muy bien posicionado es un referente y está en la vanguardia

y creo que hay que felicitarse del acuerdo obtenido entre los diversos grupos parlamentarios porque partíamos de una interpelación en la que existían muchas coincidencias en el análisis

energética que bildu planteaba en su iniciativa y de ahí que nosotros los socialistas destaquemos tres aspectos importantes de este acuerdo primero el impulso

generación en segundo lugar el apoyo a la construcción de un centro de producción a gran escala de baterías de última generación en miñano fundamentado

al gobierno vasco en la búsqueda de la financiación tanto a través de los fondos europeos como a través de su participación en el capital social del proyecto y hemos acordado también la necesaria implicación en este proyecto de las principales empresas del sector automovilístico del país y de las instituciones competentes para conseguir esa ampliación del parque tecnológico de miñano en el que implantar

y hasta la fecha los materiales con los que se fabrican las baterías proceden de asia principalmente de china y la unión europea no puede perder este tren de la competitividad la apuesta del gobierno chino data de dos mil quince con el programa made in china dos mil veinticinco con el que quiso impulsar

siendo una de las principales líneas de intervención la producción de vehículos de energías alternativas

para aminorar esa dependencia de la importación de los productos procedentes de asia y este mercado tendrá un valor anual estimado de hasta doscientos cincuenta mil millónes de euros para dos mil veinticinco

el acceso seguro a materias primas de baterías producidas de manera sostenible y con un coste razonable y también hacer de europa es el líder mundial en tecnología de baterías entre otros asuntos y ni las plantas de hungría o berlín serán las gigafactorías más grandes de europa intalvolt anunció hace tres meses una inversión de cuatro mil millónes de euros para construir una gigafactoría

de cuarenta y cinco gigavatios hora que podría llegar incluso hasta los setenta gigavatios hora

y con una primera fase en el proyecto que se prevé complementar en la primavera de dos mil veinticuatro y aquí en euskadi

que van a complementar la cadena de valor del vehículo eléctrico en españa mediante la fabricación de baterías de estado sólido en el territorio alavés y contribuir de este modo a esa estrategia europea para alcanzar en dos mil veintiocho

y se define así como un proyecto estratégico un proyecto de país para el desarrollo de la tecnología propia frente a la actual dependencia tecnológica de china la fábrica basquevolt suministrará celdas a así como a otras gigafactorías de toda europa

la digitalización y el reciclaje y una segunda vida de las baterías el proyecto basquevolt está integrado

y ha sido presentado en la manifestación de interés denominada impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial un proyecto que en su conjunto pretende desarrollar

y de carácter circular para la producción de baterías ligeras y ambientalmente sostenibles a un coste menor y con mayor capacidad y vida útil más larga

la producción de hasta diez gigavatios de celdas la fabricación

y vehículos ligeros para el reparto de última milla el ensamblaje de los propios vehículos ligeros

dándoles en algunos casos una segunda vida para aplicaciones estacionarias

aumentar la competitividad de la cadena de suministro de componentes del vehículo eléctrico impactar en esa cadena de valor del almacenamiento de energía

de los fabricantes de bienes de equipo eléctrico y otros componentes del reciclaje de materias primas también otro objetivo es reforzar la industria electrónica de potencia y la implantación de energías renovables

una ventaja competitiva decisiva ante la penetración de los países asiáticos en su cadena de valor y por eso euskadi presentó a finales del año pasado

con baterías de nueva generación para la construcción de la fábrica de baterías el gobierno vasco ha solicitado la ampliación del parque tecnológico de álava en miñano

de ahí que instemos en ese acuerdo al que hemos llegado a las instituciones competentes a aprobar esa ampliación una de las claves para implantar la fábrica en álava

y el desarrollo de sus líneas de investigación en la construcción y prueba de la batería sólida clave en su aplicación a la automoción el cic energigune destaca por su capacidad en la fabricación de las celdas

para cerrar todo el proceso de extracción de materias primas para la construcción de celdas el ensamblaje de baterías y el reciclaje de estas una vez agotadas

en una línea de trabajo colaborativa con importantes empresas y con otras comunidades como extremadura y navarra el proyecto comprende toda

hasta la construcción de celdas en basquevolt el ensamblaje de baterías en navarra y el reciclaje de unidades de carga

su primera vida los integrantes del consorcio battchain llevan varios años desarrollando tecnologías y perfilando también modelos de negocio para implementar

económicamente viables y sostenibles en el tiempo por eso otro acuerdo importante es el del apoyo al gobierno vasco en la búsqueda de la financiación del proyecto

tanto con esos fondos como participando del capital social para la consolidación de este proyecto

el arraigo y garantizar el interés general los proyectos de gigafactorías en europa y españa son y serán un foco de oportunidad porque la previsión es que la demanda de baterías en dos mil treinta sea de setenta y cinco gigavatios

y la pugna territorial en el estado y ya lo han comentado algunos portavoces que me han precedido esa pugna en el estado por contar con dos o tres gigafactorías va a ser dura muy dura

en centros de automoción o la implicación incluso de las instituciones y hay que posicionarse bien para obtener los resultados deseados

y tenemos importantes oportunidades por eso hay que tener en cuenta que más del ochenta por ciento de las empresas vascas más grandes de mayor dimensión se van a ver afectadas por el sistema de propulsión el powertrain y el sistema de guiado el drivetrain y solo dos

decía la consejera en aquella interpelación por eso este proyecto es todo un reto tecnológico

hay un compromiso participativo de varias e importantes empresas y de ahí que se necesite trabajar e implicar a las principales empresas también del sector

al acuerdo de euskal herria bildu porque sin duda esto va a fortalecer

esperamos que se lleve a buen término y que nos permita afrontar las transformaciones que van a hacer de palancas en la recuperación económica social y territorial de euskadi

que conseguimos hoy que es muy importante para el proyecto sobre todo para la modificación urbanística en el ayuntamiento de vitoria gasteiz lo que le da fuerza a este gobierno es eso esa palabra que es un poco pomposa que utilizamos mucho aquí que es

una cimentación haya un entorno favorable al proyecto y el principal activo del proyecto en estos momentos allá cuando mandemos el expediente a bruselas es que existe energigune desde hace diez años investigando todo lo que tiene que ver con el almacenamiento energía yo no sé si todos somos del todo conscientes de lo que tenemos

de los centros tecnológicos de investigación de almacenamiento de energía en europa y es el más importante en números en números que ahora daré en cuanto a publicaciones tienen seiscientos publicaciones en el año precovid que tomaré como referencia trece patentes registrados

y participan ya en las dos principales líneas de investigación en europa que son las batteries europe y battery dos mil treinta

no tiene nada parecido el resto del estado no tiene nada parecido italia no tiene nada parecido lo tenemos en euskadi y yo creo que es una estrategia y un

las empresas como cegasa y demás que generan ese cultivo

se solidifica en proyectos como este energigune es un centro que representa como ningún otro el modelo de desarrollo tecnológico de euskadi que somos es una estrategia de perro pequeño pero listo somos

y una vez que tenemos localizado un nicho donde no se

y voy a teatralizar un poco el gobierno se reúne con las empresas y lo que hace es decirles a la empresa bueno

como no os queréis fusionar lo que vamos a hacer es externalizar en parte

en un centro por ejemplo como energigune pero también en el sector de la automoción a donde se han ido más podemos y pp el centro

es una forma muy inteligente de crear sinergias entre las empresas

con empresa con los gigantes que hay que hay en el mundo sobre todo

en investigación básica que es la que menos frecuente es en las empresas porque

accesible dedicarse a lo inmediato al próximo modelo

de coche errotzeaz askotan

por tanto es una jugada perfecta que engloba todos los trending topics de la nueva política engloba

kilómetro cero refuerza la colaboración público privada ayuda al arraigo de las empresas y será un motor tractor un proyecto tractor para toda esa industria de la automoción que es tan importante

la mayoría espero que esté ya en ese estadio pero hay que ayudarle a pensar de que esto no es futuro de que es

argumentos que parecían de actualidad hace seis meses ocho meses de que

escapar su negocio de que hay lobbies muy importantes en favor de los combustibles fósiles esos argumentos que decían que los coches eléctricos no se venden se producen pero no se venden la gente no los quiere esos todos van a caducar

y por tanto tiene que ser esta gigafactoría una especie de panel publicitario gigante donde le digamos a nuestros propios industriales que esto es el futuro ya lo saben eh la mayoría de ellas pero vamos convencerle porque

concretos pero me consta que todavía hay gente que se aferra a lo que mejor sabe hacer y

y en este ámbito van a ser están siendo ya disruptivos y que cuando se inventa el avión nadie va en barco pues esto es un poco así y hay que ayudarle

todo eso el partido popular y podemos han expuesto un punto de vista que para mí es algo así como para no fracasar no hay que intentarlo y hay que

están escritas claro que luego habrá que encontrar compradores para las baterías pero

exigible a cualquier gobierno que no esté atenazado al miedo a fracasar y que incluso se le dé un cierto margen más allá de la crítica política legítima y lógica que tiene que hacer la oposición se le dé al gobierno un cierto margen

y después si no sale ya se explicará por qué no ha salido pero creo que esa mentalidad de para fracasar no hay que intentarlo

no es buena para euskadi hemos sido otra cosa en el pasado y tenemos que volver

en esa dinámica termino ya la idea que quiero transmitir hoy es que la primera piedra

de la hipotética futura gigafactoría en miñano la puso el gobierno vasco y las empresas que participan de energigune hace diez años en ese

en esa trayectoria bien orientada estratégicamente hacia un nicho de mercado

tienen el problema de la intermitencia en el suministro y por tanto se veía que había que mejorar las capacidades de almacenamiento para hacer posible que en el mix energético las energías renovables tuvieran más peso

de hecho se puede decir que el debate de hoy es

como la primera piedra que se puso en energigune pero es un hito importante que pasa

político que hará posible que en araba y en el resto de euskadi también

lo cual es toda una noticia bukatzeko azaldu erdaraz

buenas tardes en los próximos meses en los años venideros casi inmediatos nos jugamos el futuro de generaciones enteras no cabe duda de que nos encontramos en un momento histórico un punto de inflexión para el país vasco para el resto de españa y también para occidente en general

la obligación de construir un nuevo mundo hoy cuando ese modelo parece llegar a su fin nos toca a nosotros dar el paso y transformarnos para seguir estando en la vanguardia dicho esto por supuesto que apoyamos la instalación de la gigafactoría álava se la juega más que nunca a ese proyecto

sostenemos la actual crisis económica con el pulmón del dinero público pero cuando eso se acabe solo nos quedará un camino devolver la deuda gracias a que somos capaces de generar o arruinarnos por haber perdido el tren de la historia la crisis de la covid diecinueve nos ha demostrado que la fragilidad de nuestro sistema productivo es notable y que no podemos quedarnos parados viendo cómo otras naciones se fortalecen mientras nosotros nos vamos quedando progresivamente atrás en vox defendemos

la queremos reforzar a toda costa y apostamos decididamente por convertir a españa en una referencia de nuevo no por ello debemos dejar de lamentar la nefasta

que ha convertido el asunto de los fondos en una carrera entre autonomías ni hay plan ni hay programas no hay capitán que gobierne el barco hoy hay por lo menos diez autonomías luchando por este proyecto y es que este asunto es clave pues si en algo somos referencia en españa es en

no en vano estamos en el top diez de los fabricantes mundiales en este sentido álava tiene una posición estratégica favorable

así como las infraestructuras necesarias para surtir a muchas más fábricas si fuera preciso algo que por supuesto también deberíamos impulsar a posteriori tenemos posibilidades y creo que podemos volver a ser un punto claro y vertebrador para el resto de españa renunciar a ello dicho esto en vox celebraremos si esa gigafactoría se instala en álava en lo único que no coincidimos es en que el gobierno intervenga y sea socio en este proyecto

cuando el gobierno interviene con su capital generalmente nos podemos quedar sin dinero y sin empresas eskerrik asko martínez andrea

de apuntes sin ánimo de convencerle más allá de lo de razón de lo razonable eh pero

de la apuesta por la electrificación del vehículo privado y nosotros entendemos que esto no tiene porqué ser así quiero decir que en general las reflexiones que usted hacía

sobre los cambios de modalidad del transporte de masas etcétera la menor utilización de vehículo o la menor existencia de vehículos privados en el futuro nosotros eso lo compartimos pero usted tiene que tener en cuenta que a día de hoy tenemos según el observatorio de coyuntura energética la edición

tenemos un millón trescientos setenta y uno mil vehículos

y camiones pequeños y furgonetas de reparto etcétera es decir que si en el futuro nos vamos a una movilidad compartida por ejemplo o

del cambio de modalidad que pueda haber o más allá de la superación en parte del modelo

tiene que atender a la electrificación del parque móvil en general o por lo menos del parque móvil ligero también autobuses por qué no irizar está por medio pero no tiene porqué incidir en lo que usted estaba diciendo en cuanto

excede un poco el marco nosotros veníamos a hablar de una cuestión concreta entendemos que el proyecto de la gigafactoría necesita un impulso necesita un impulso ahora en el contexto de la tramitación y negociación de los fondos

entendemos que este es el momento o sea ahí sí que le he visto que comparte con el pp y con ciudadanos esa reticencia de pues no está claro si hay algunas empresas que se van a sumar no está claro si es la mejor opción bueno pues nosotros lo que les pedíamos en esta

es que precisamente lo que hagamos sea una apuesta por una apuesta por y ya se irán desarrollando y el señor gil vegas también decía

no se acierte por la tecnología concreta que va a triunfar en el futuro pero eso le está pasando a todo el mundo y la apuesta hay que hacerla igualmente y las apuestas se están haciendo igualmente es decir usted no puede tener esto no va a ser algo fijo y además a la velocidad que está evolucionando la tecnología

de hecho yo creo que la gigafactoría que se pretende instalar dentro del proyecto global de o lo que fuera no está pensado en una tecnología

de hecho este proyecto se puede empezar a construir modularmente de manera que incluso se pudiera empezar con las baterías de ion litio líquido actuales para pasar a las de estado sólido

ya está desarrollando incluso los siguientes que superan el litio porque es digo pionera tienen número uno en investigación en baterías de sodio os estaba hablando de baterías metal aire estaba hablando de muchísima evolución que va a estar

desarrollo tecnológico pero lo que sí es importante es en este momento crear el centro de producción de almacenamiento energético a través de batería a gran escala eso es lo que está en juego y después ya tendrá ese centro o ya

de adaptarse y evolucionar a la tecnología que va a necesitar o usted cree que

entendemos que es el momento de apostar y es el momento de subirse riesgos evidentemente siempre hay

se nos vayan a sumar tampoco las hay mercado suficiente y necesidad de electrificar por lo menos todo el parque de vehículos no pesados

señor otero los esfuerzos decirle que no nos oponemos al proyecto lo he dicho en mi primera intervención pero sí que creemos que hay

a corto medio y largo plazo especialmente a largo plazo creemos que un proyecto porque aquí

básicamente hace constar respecto a su modelo de negocio y respecto a su cadena de valor en la producción de estas baterías y aquí las dudas que existen es respecto a si finalmente esta cadena se va a producir o no es decir la intención existe pero a día de hoy desconocemos si efectivamente

el litio necesario para esta operación obviamente entendemos por la apuesta del gobierno vasco que sí se construirán aquí las celdas de las baterías y

y su reciclado en navarra también está en duda lo que

interesado en la compra de dichas baterías es la empresa sovic de sevilla

que fabrica pequeños vehículos de reparto de mercancías de última milla como se ha dicho eso es básicamente la certeza clara que sí que existe respecto a esta cadena de valor

y posterior venta del producto y teniendo

a la vista de que no hay intención de realizar un plan de viabilidad que aborde la oportunidad o no de este proyecto lo que nos sorprende es que lo que sí que se sepa es que

empleos eso sí que se dice y muy rápido dice que se van a generar diez mil empleos con este proyecto

hay que hablar de la necesidad de un plan estratégico que aborde la diversificación del sector no creemos que más allá de que este pueda ser un proyecto concreto que permita hacer frente al actual parque móvil aunque creemos que esta gigafactoría va a ir más ligada a la exportación que a la sustitución del parque móvil pero en cualquier caso decir que si va dirigido hacia eso puede ser una vía pero creemos que debiese de haber y que para apoyar esta debiesemos de saber si el gobierno vasco se dispone a explorar otros proyectos que lo acompañen porque si no

en el mismo cesto nos parece preocupante si además tienen que ver con

la conversión del parque de vehículos de combustión a este modelo creyendo usted comparte señor otero que el futuro y además así lo plantean los objetivos que fija la unión europea pasa por la conversión hacia

público y en este caso sí con baterías de esas características ojalá pudiesemos ir también en esa dirección en euskadi y creemos que debiese ser esa una apuesta y que también hubiese podido plantearse la necesidad digo de ese plan estratégico

chocante estamos convencidos de que por su parte señor otero

fin si hay tantas certezas de que este proyecto tiene virtualidad de tener éxito que impide que previamente se haga un análisis respecto a las oportunidades y respecto a la necesidad o no de ir en esa dirección y si parejamente debiesen de focalizarse esfuerzos por parte del gobierno vasco en otros

estamos tratando de recibir financiación por parte de los fondos europeos pues efectivamente intentemos hacer ese plan estratégico que

en más de una ocasión pero que llega tarde y que ahora si estratégicamente no abordamos nuevos nichos de conversión en este sentido difícilmente a medio plazo podremos alcanzar los objetivos que hubiesemos de cubrir

no creemos tampoco por otro lado que haya que sustituir todo el parque móvil existente supongo que en eso también habrá acuerdo en que básicamente lo que hay que hacer es reducirlo drásticamente y el que quede en su caso que debiese ser el mínimo posible

en fin creo que abordar la cuestión como un trasvase directo de batería

en el mercado de tantas baterías eléctricas por tantos vehículos móviles

deje de haber tanta necesidad de vehículo privado

de baterías también eléctricas en su caso porque también estas son finitas respecto a los recursos medioambientales eskerrik asko

no se trata de no intentarlo para no fracasar se trata de hacerlo bien

mire que no sea por nosotros nosotros vamos a votar que sí al proyecto vamos a votar que sí a su transacción

a nuestro modo de entender la forma de hacer bien las cosas en este tema

primero investigar la tecnología en colaboración con universidades y empresas hasta definir un prototipo viable y un proceso de fabricación claro después de hacer un buen acuerdo con fabricantes es decir con clientes y después montar la fábrica

y pide setecientos siete millónes según el dossier del treinta de noviembre y con nuevos datos de ayer ochocientos ochenta y dos

es decir ese es uno de los primeros problemas que vemos y repito vamos a votar que sí

porque aquí hay algo más que riesgos razonables esto no es solamente

resulta fácil apostar en esos niveles de inversión con la pasta de los demás esto suena a proyecto faraónico que hay que hacer con muchísimo cuidado y estoy de acuerdo energigune es muy valioso de acuerdo pues escuchemos lo que dice

entonces está bien intentarlo pero es que ojo con el fracaso porque es que esto no es gratis y aquí no estamos jugando poco dinero

entiendo que la propuesta de hacer la fábrica en vitoria responde a la idea de suministrar las baterías a mercedes

pero si es que repito el acuerdo con mercedes no está cerrado está difícil

y la ubicación debería de contemplar los menores costes logísticos posibles de cara a la exportación que seguramente será donde terminen vendiéndose las baterías por ejemplo deberíamos tener una buena conexión

y marítima por eso nuestro grupo ha presentado una enmienda que a lo que insta es a liderar e incrementar la financiación de la investigación es decir empezar a hacer las cosas desde el principio

pero ponemos por otro lado fomentar la colaboración público privada entre los diferentes actores de euskadi para convertir a la comunidad autónoma

teniendo en cuenta que las baterías no sirven para nada solas tienen que ir montadas en vehículos y si los fabricantes de los vehículos no las compran es decir no basta con el argumento de decir van a faltar

esto no es así hoy faltan hay en marcha

cuando queramos tener la fábrica hecha no faltarán y en ese momento

de la mano de los fabricantes seguramente tendremos problemas a medio y largo plazos

al peso de las baterías y a la dificultad de transportes por eso en la fase de diseño es fundamental tener en cuenta el sitio bueno por lo demás

son altamente contaminantes tienen difíciles procesos de reciclaje y son peligrosos a la hora de almacenarlos y esto son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación bien

se hace o se puede hacer o se está haciendo en otros sitios en europa con altísimos costes

hay que estudiar los requisitos medioambientales existentes y las necesidades para asegurar

no obstante repito votaremos a favor de la propuesta porque nos parece que se ha redactado en términos adecuados y

porque creo que hay que rematar con un par de pinceladas primero señalar que nadie ha pedido un cheque en blanco a ningún grupo parlamentario en el tema de la gigafactoría y su creación

tecnológico de miñano es verdad que las dudas son lógicas las

mucho por hacer mucho por decidir pero es que

bastantes años esto se trata ya de una estrategia política y económica en la que yo creo que no debiéramos perder

porque si no no tendríamos manera de encajar o de encajarnos en el futuro más cercano que es el del vehículo eléctrico también hay un trabajo proactivo desde el gobierno vasco realizado ya desde hace también muchos años

con centros de investigación centros de innovación y centros tecnológicos que me parece que no debiéramos perder la oportunidad de aplicar todo lo que saben y todo lo que han hecho hasta ahora tenemos la oportunidad hoy hoy es la oportunidad ese futuro se está jugando ya

para realmente dar la oportunidad a este proyecto un proyecto que además no es único ni exclusivo esto pertenece a un conjunto de trece

a trabajar desde el plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de españa y de esos trece proyectos cinco son perte cinco son proyectos estratégicos de transformación y recuperación

por tanto creo que este es el momento y por eso creo que no podíamos perder este tren yo sí pediría no nos lancemos piedras contra nuestro propio tejado hagámonos competitivos sepamos vendernos bien y sepamos hacer las cosas bien y luego venderlas porque nuestros competidores lo están haciendo

ni en solitario por eso de verdad agradezco la disponibilidad de euskal herria bildu a llegar a un acuerdo también agradezco

esa enmienda transaccional yo creo que la apuesta es más que económica esta es una apuesta

para conseguir ser una palanca y tener una recuperación económica social y territorial en euskadi que junto con otros proyectos similares a este

baimenarekin legebiltzarburu andrea bueno no hoy no es el momento de tocarle

gobernuak ateak zabalduko dizuetela a quien sí le voy a tocar alguna palma es al partido popular ciudadanos

en el caso de podemos esta mentalidad de hasta tenerlo todo bien atado no vamos a avanzar en el proyecto

y el tren pasa ahora y yo sí me

de la medición y de la valoración de riesgo que hacen todas las empresas que acompañan el proyecto

de la del gobierno pero me fío mucho de la que hacen

el nivel de incertidumbre que rodea este proyecto parece ser que es similar a cualquier otro proyecto empresarial porque la certidumbre total en empresas saben ustedes que no existe y bueno ha dejado usted señor gil hasta el último momento su posicionamiento va a votar a favor

de las gigafactorías en general el uno de marzo han presentado en el senado una iniciativa

solicitando instando al gobierno que presente el proyecto de gigafactorías en tres comunidades autónomas en galicia en barcelona y en extremadura se les ha olvidado álava quizás porque el que lo solicitaba era un senador